enpresaren langileei la empresa

realizaba subcontratada un servicio para la empresa euskaltel concretamente

de fidelización y retención de clientes paradójicamente esta empresa destinada a fidelizar y a retener los clientes de euskaltel no fue capaz

el contrato con euskaltel y de mantener esta relación comercial fruto de la ruptura del contrato con euskaltel el siete de noviembre de este año

la decisión de la resolución de noventa contratos y por tanto de despedir a noventa personas en esta empresa fundamentalmente trabajan mujeres

abunda la precariedad y los bajos salarios esta empresa está bajo el convenio estatal de telemarketing que no contempla la subrogación de la plantilla en el caso de cambio de empresa

aunque les da una preferencia en la contratación en la empresa nueva que entre a realizar ese servicio sin embargo esa preferencia no les

adquiridos y por tanto empezarían de cero sin antigüedad sin vacaciones sin pluses sin nada convirtiéndolas en eternas becarias en eternas precarias y por ello hoy estas trabajadoras nos piden

convenios de ámbito territorial que protejan efectivamente los derechos y que pidamos a empresas como euskaltel que en las condiciones de subcontratación incluyan también cláusulas

mientras dure vuestra lucha legítima en defensa de vuestros puestos de trabajo

benetan gaur egun euskaltelen enpresan dauden barne orekak aldatzen hasiko bagina el detonante de la interpelación y de la posterior moción sobre euskaltel que no es un teme nuevo pero sí se plantea en términos nuevos en los últimos tiempos fueron unas declaraciones del consejero delegado de zegona realizadas en una junta de inversores

en las que ponía encima de la mesa la posibilidad de poner en el mercado la red de fibra óptica de euskaltel esto no es como en la película una amenaza fantasma sino que es una amenaza concreta muy real con nombres y apellidos

hay un gran volumen de capital actualmente detrás de los inversores de infraestructuras que ahora están mirando a las telecomunicaciones la red de euskaltel es una red de máxima calidad y va a ser muy atractiva en términos de valoración cuando hay un gran volumen de capital en fondos que está mirando

estoy seguro de que el consejo de euskaltel y los directivos de euskaltel a la hora de mirar fórmulas de creación de valor durante los próximos años serán conscientes de esta posibilidad

es propiedad en un sesenta y ocho por ciento de las cajas y un siete coma cinco por ciento del accionariado es del gobierno vasco que además cede el uso mediante alquiler

en los años anteriores durante años euskaltel desempeña su actividad como una empresa que más allá de su tarea estrictamente mercantil genera una fuerte empatía con el entorno y se convierte en una empresa de país a través de su propia práctica comercial y de otras actividades como por ejemplo

y un compromiso con el país con el euskera y con nuestras tradiciones expresado una y otra vez esta trayectoria empieza a cambiar a partir del año dos mil doce cuando

de ese año se decide por parte del gobierno vasco vender a euskaltel la red de fibra óptica y vender también sus acciones para posibilitar

esa empresa que había sido mayoritariamente pública y de las cajas a partir del año dos mil doce pasa a estar controlada básicamente por dos fondos de inversión especuladores esos fondos ponen en marcha toda una serie de mecanismos de generación de valor a corto plazo de lo que fuera a costa de la externalización de la plantilla que se reduce en más de un treinta por ciento a costa de disolver el equipo ciclista a costa de fomentar

etcétera etcétera son tres años de neoliberalismo en estado puro dentro de euskaltel que culminan con la salida a bolsa de la empresa en el año dos mil quince estos dos fondos buitres se reparten unos beneficios de más de quinientos millónes de euros

la plusvalía entraron pagando ciento cincuenta millónes vendieron por más de seiscientos y por si esto fuera poco pidieron un crédito de doscientos millónes que se repartieron religiosamente

hay que recordar que cuando el gobierno privatiza la red de fibra óptica se la vende a euskaltel para hacerla más atractiva para estos fondos y también privatiza sus acciones se nos habla de una empresa en peligro

a orange por un desacuerdo en cuanto a la utilización de la red de esta empresa francesa y al final esa condena de doscientos veinte millónes

ineludible para afrontar ese proceso de privatización en dos mil doce doscientos veinte millónes podían poner en peligro el futuro de euskaltel en dos mil quince

para repartírselo en forma de dividendo esta es la estafa que a la sociedad vasca los espabilados de estos fondos pero la cosa como todos y todas conocemos sigue una vez que la empresa está en bolsa inicia una serie de adquisiciones de otras empresas de la cornisa cantábrica concretamente la empresa r cable de galicia y la empresa telecable de asturias bigarren enpresa honetan

kutxa una vez que zegona entra en el accionariado con un quince por ciento y dispone de doscientos millónes para invertir siendo zegona un fondo de inversión cuya única actividad era precisamente primero ostentar una participación

dentro de euskaltel era innevitable que zegona tratara de ampliar su participación como así fue

en el accionista mayoritario de euskaltel controlando un veintiuno por ciento y empresa en la cual contó con la inestimable colaboración de kutxabank

iba deshaciéndose de acciones hasta quedarse únicamente en un diecinueve por ciento por tanto apiriletik bi mila hemeretziko apiriletik zegona da

sartu dute la elección del nuevo consejero delegado de

garcía fernández nos muestra las intenciones de este fondo

esta persona josé miguel garcía era el anterior presidente de empresa que consiguió engordar lo suficiente como para dar un pelotazo venderla a otra empresa mayor y desapareciendo la empresa hacer ricos a sus propietarios

y para eso necesita expandir la empresa en el estado para ganar ese atractivo y para

la opción de la venta de fibra óptica sería en ese plan una posibilidad de incrementar el capital con el que financiar esa expansión siempre en aras al objetivo final de la venta y del pelotazo

sektore honetan necesitamos que euskaltel vuelva a ser una empresa de país que ejerza un liderazgo tecnológico

productivos de este país necesitamos una empresa comprometida y no necesitamos una empresa que sea pasto de los especuladores

enpresa bat hemos planteado una moción que busca el cambio en los equilibrios dentro del consejo de administración de euskaltel para volver a situar a esta empresa en el carril del que nunca debió salir

con el país con su tejido productivo y con su sociedad parece ser que esta propuesta no va a reunir los apoyos suficientes sin embargo hemos visto

enmienda presentada por parte de los grupos que apoyan al gobierno un cierto tono novedoso en principio esta enmienda tiene todos los ingredientes que

no da plazos no adopta compromisos concretos y no habla de cantidades monetarias sin embargo desde nuestro grupo queremos interpretarla como un cambio en el discurso del gobierno vasco o al menos de los partidos que sustentan al gobierno vasco esta enmienda nos pide instar al gobierno vasca a analizar con profundidad la compra de participaciones de euskaltel al objeto de garantizar

la venta de red de comunicaciones de euskadi vamos a mantener

votaríamos a favor de esta enmienda porque entendemos como decía anteriormente que supone un amago por lo menos un principio de cambio en el discurso

a una inversión dentro de euskaltel y a un cambio de política de una política que hasta ahora ha sido la pasividad la resignación y el esgrimir que no se puede hacer nada a un reconocimiento de que al menos hay un tema

es porque hay una posibilidad entendemos que desde ese análisis la única conclusión lógica si realmente queremos

la decisión de compra que hoy estamos proponiendo si no se aprueba hoy

que fruto de esa reflexión del gobierno vasco en el futuro llegue la inversión necesaria para mantener

antes de comenzar quisiera no desperdiciar la ocasión

condenar el golpe de estado que ha vivido el pueblo de bolivia esta misma semana ha sido un lapsus pero me parece una cosa seria

para este tipo de expresiones porque es realmente grave lo que está pasando en bolivia

la ocasión quiero saludar también a las trabajadoras de

ellas y también otras trabajadoras el problema que están viviendo en estos momentos es precisamente consecuencia del asunto que debatimos hoy con la moción que nos trae el señor casanova

en otras ocasiones y que tiene que ver con el devenir de la empresa euskaltel y de la red de fibra óptica dos elementos ya lo hemos dicho nosotros en otras ocasiones que creemos que son dos elementos estratégicos

pero sobre todo porque son dos elementos que fueron construidos

con dinero público fueron construidos con el dinero de la sociedad vasca y que ahora responden a intereses privados y la consecuencia de esto

está siendo los problemas laborales que están sufriendo estas trabajadoras y yo por eso

saludarlas nosotros también estamos preocupados por el futuro de la red de fibra óptica por el futuro de esa red de telecomunicaciones que encabeza el título de la moción

de eh bildu estamos preocupados como décimos en nuestra enmienda

si es vendida a un tercer actor privado porque es verdad que eso supone un desarraigo

para nosotros no sería suficiente que esa red siga siendo propiedad de la empresa euskaltel si la empresa euskaltel no cumple una serie de requisitos si la empresa euskaltel como hasta ahora tras todo su proceso privatizador

a intereses exclusivamente privados de sus accionistas que en su acción en la empresa estamos viendo qué políticas se está llevando

y el señor casanova ha hecho referencia a algunas de ellas y yo no quisiera repetirme pero estamos viendo cómo se estruja a trabajadoras y trabajadores para aumentar los beneficios de unos pocos en esta empresa y ese es el origen del asunto en nuestra opinión el traslado de unos recursos públicos a favor

privados y esto tiene responsables y nosotros creemos que también hay que decirlo y en el caso de la red de fibra óptica es muy claro

se tomó la decisión un verano de una manera bastante urgente y hay que decir que partido nacionalista vasco partido socialista

de aquella venta y hay que decir que los gobiernos que hemos tenido en este país tanto del pnv como del partido socialista

y por lo tanto pensamos que son responsables en última instancia de la política que ha venido desarrollando euskaltel con consecuencias para el empleo nosotros incluíamos en nuestra enmienda la cuestión del impacto sobre el empleo porque estamos viendo muy claramente cómo

nociva para el empleo tanto en lo que tiene que ver con destrucción de empleos para aumentar beneficio del capital como en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo el modus operandi y creo que el caso de esta empresa que están hoy aquí sus trabajadores presente gss creo que es

clarísimo el de ofrecer parte de los servicios de la empresa a través de empresas subcontratadas externalizadas

esto sin duda generará mejores condiciones desde el punto de vista económico a la empresa pero se hace de precarizar las condiciones de trabajo se hace a costa de una gran inestabilidad en las trabajadoras y trabajadores que trabajan al final de manera directa o de manera indirecta en este caso

euskaltel por lo tanto nosotros pensamos que la solución a esta cuestión no pasa solo por mantener la red de fibra óptica en manos de euskaltel si no hay cambios también en las políticas de euskaltel

del segundo punto de la moción de eh bildu nosotros estamos de acuerdo

con las afirmaciones o con los objetivos que en él se plantean pero pensamos también que eso no es posible de hacer si no

a una empresa privada con intereses privados nosotros pensamos que mientras

público y una potente propiedad pública de esta empresa esto no va a ser posible por eso nosotros insistimos una vez más en esta cuestión pensamos que es una empresa estratégica y pensamos que la única

de garantizar que esté al servicio del interés general en un sector estratégico y que respete las condiciones de trabajo

ya sea las trabajadoras que en estos momentos tienen contratos a través de empresas indirectas la única manera es el control

estamos convencidos de esto y por eso planteábamos nuestra enmienda a la totalidad la defenderemos también es verdad que la enmienda que plantea el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi no niega el riesgo

de fibra óptica y a nosotros esto nos parece importante y además plantea que se estudie esa posibilidad de adquisición de participaciones en la empresa

a decir que los pequeños pasos no sean positivos pero son pasos

y nosotros pues desconfiamos desconfiamos porque pensamos que quienes

a acometer el proceso que nosotros creemos necesario para revertir esas privatizaciones pero es verdad que es difícil negarse cuando alguien abre la mano a pequeños pasos yo el otro día corrí la behobia san sebastián

mi buen amigo javier laguardia que salió paso a paso

es cierto es cierto que también ambos llegamos a la meta

pero si no tiene voluntad de seguir dando los pasos necesarios para llegar no se llega y esa es la duda que nosotros tenemos si el partido nacionalista vasco y partido socialista son partidarios de que euskaltel

un control público potente porque esa es para nosotros la solución tanto para que un sector estratégico pueda servir al interés general

más cuando esa empresa ha sido generada con dinero público y pueda servir a que haya unas condiciones de trabajo

sí gracias presidenta egun on denoi la moción que bildu nos ha planteado
en el debate de hoy parte efectivamente de una interpelación que le planteaba el señor casanova a la consejera

y venía a decir la interpelación qué pensaba hacer el gobierno vasco para que la red de telecomunicación construida en gran medida con dinero público

se quedase en la empresa euskaltel y hoy la propuesta a debatir los objetivos que pretende el señor casanova

a su interpelación además no partimos de un punto cero ni sobre las manifestaciones ni respecto a las acciones realizadas por el gobierno vasco sobre euskaltel y con euskaltel y tampoco sobre los acuerdos adoptados por el propio parlamento en relación con lo que ha sido es y será seguramente esta empresa

acciones específicas sobre el arraigo de empresas tractoras y estratégicas de euskadi y también específicamente lo que se refiere a la empresa euskaltel en este parlamento hemos acordado a finales de mayo no tomar en consideración la proposición de ley de bildu

hemos debatido en esta cámara sobre la participación del gobierno vasco en empresas tractoras y ante una proposición no de ley sobre medidas a adoptar

de euskaltel este pleno del parlamento vasco acordó instar al gobierno a que utilice

para que euskaltel tenga el máximo nivel de arraigo en el territorio vasco en aras a garantizar el compromiso con el empleo la inversión la investigación el avance tecnológico y el desarrollo de euskadi por tanto

que decía instar al gobierno vasco a mantener y mejorar las capacidades competitivas de euskadi para lograr optimizar el atractivo de este territorio como un territorio

y se instaba al gobierno vasco a kutxabank y a las tres fundaciones bancarias propietarias del banco teniendo como objetivo un modelo productivo

en el país vasco a desarrollar una política de inversiones significativa y sostenible en las empresas estratégicas para garantizar su vinculación al territorio y asegurar la capacidad de permanencia y la decisión en este país

se ha instado al gobierno y a otras entidades significativas en esta materia a mantener una actitud siempre proactiva y está bien ser vigilante sobre lo que ocurre

en el tejido productivo vasco por parte de quienes tenemos responsabilidades políticas y de gestión del gobierno pero lo que no se puede negar es que el gobierno vasco

con acciones de gestión y de colaboración en el caso concreto de euskaltel que son importantes para el mantenimiento de esta empresa

y lo decíamos en alguna otra ocasión los socialistas estamos ante una empresa del siglo veintiuno y queremos que euskadi sea un territorio competitivo económicamente y atractivo

no solo para que las empresas se instalen y desarrollen en euskadi sino para que mantengan el arraigo cuando se trata de empresas estratégicas y tractoras

de la compañía de euskaltel se aprovechó para modificar los estatutos de esta compañía con el fin de garantizar una serie de elementos que se consideraban fundamentales

habría que hacerlo cómo exigiendo también un porcentaje excepcionalmente elevado de aprobación de los acuerdos que están ligados al arraigo esos estatutos

en el momento antes de salida de la empresa a bolsa y cuando hablamos de arraigo hablamos de domicilio social del objeto social de la marca de la efectiva administración y dirección de la sociedad en euskadi que comprende además la sede social la obligatoriedad de celebrar las juntas en euskadi

el mantenimiento de los centros de trabajo el mantenimiento de los medios materiales y en definitiva el desarrollo de la actividad del operador de telecomunicaciones en euskadi y la propiedad

y hemos debatido en esta cámara en diversas ocasiones como decía anteriormente sobre la vinculación territorial de la empresa en euskadi sobre las garantías de esa vinculación

sobre la planificación para el fomento de la inversión pública en empresas

y sobre las medidas a adoptar para afincar en la comunidad autónoma vasca

y otras empresas estratégicas también importantes para este país y en diversas ocasiones también

comprar títulos de euskaltel si fuera preciso para garantizar o para facilitar un futuro más sólido

y es en el contexto de la orientación política del gobierno vasco hacia la adquisición de compromisos claros y de tener una visión estratégica en el marco competencial que corresponde en el que los socialistas vascos compartimos las reflexiones que realizó la consejera el pasado veinticinco de octubre cuando planteaba que euskaltel

es una empresa importante para garantizar la digitalización del tejido productivo vasco también es una empresa importante para garantizar el equilibrio territorial de euskadi porque para tener una posición

es indudable que hay que tener empresas potentes empresas tractoras implantadas e implicadas en el territorio y con el tejido también empresarial vasco y el trabajo de euskaltel

en euskadi y eso se ha dicho por activa y por pasiva y ya hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones que queremos un futuro marcado por el arraigo y el crecimiento de euskaltel y además ya propusimos la preferencia por un socio industrial en euskaltel que le permitiese crecer anclada en euskadi

claro que sí lo dijo la consejera lo dijimos los socialistas porque esta no ha sido ni la primera ni la segunda ni la tercera vez que hemos estado hablando de euskaltel en esta cámara

que en estos momentos tiene la mayor participación pero no la participación

no la mayoría del capital del accionariado en la empresa euskaltel el veinticinco por ciento del posible bloqueo de decisiones como el traslado del domicilio social

y a una serie de pequeños accionistas que tienen el veinticinco por ciento que permite ese bloqueo la decisión sobre la venta o no de la red de telecomunicaciones

es del consejo de administración de euskaltel y ese consejo de administración no ha adoptado hasta la fecha ninguna decisión al respecto

ningún planteamiento en el seno de ese consejo fueron unas manifestaciones a los medios de comunicación unas manifestaciones y un desiderátum punto pelota no ha habido más en ese consejo de administración y la propia empresa a través del ceo ya ha manifestado también públicamente que no se había planteado la venta por eso nosotros creemos que no se puede especular sin base cierta y sobre todo porque determinados asuntos y debates pueden hacer que se promueva un cierto interés especulativo

estamos favoreciendo así que compartimos con la consejera la reflexión que realizó al decir que el problema que existe debe plantearse en sus justos términos

con eficacia ese porcentaje del veinticinco por ciento que impide esta y otras posibles operaciones como el desarraigo está en manos vascas

está garantizando la imposibilidad de esa operación y de otras posibles operaciones y somos muy conscientes de la importancia de euskaltel en el tejido productivo vasco

el pasado pleno de control es el trabajo que el gobierno vasco ha desarrollado con euskaltel en la ampliación de la red a los polígonos industriales con diversos planteamientos y soluciones técnicas la consejera dijo euskaltel es hoy un agente implicado y relevante no solo en la digitalización general sino también en la llegada a los núcleos rurales

sí lo es la garantía del equilibrio territorial y de ahí deviene la importancia de su presencia en euskadi

a diversos planes y orientaciones que el gobierno quiere dar como es la participación en empresas estratégicas y tractoras hoy hemos planteado una enmienda como decía usted señor casanova en la que

profundo de cómo debiera ser si es que llegase el caso esa participación del gobierno en euskaltel pero esto no va a remover los cimientos como usted pretendía dar al menos en su discurso no va a remover los cimientos de la estructura de la empresa euskaltel no se propone eso usted sabe cuáles son

de la participación en empresas estratégicas y tractoras porque queremos ese arraigo porque queremos que estén en euskadi porque queremos que se desarrollen en euskadi y queremos que se desarrollen con euskadi y con el tejido productivo pero evidentemente es un pequeño paso

si se diera el caso de que vamos a participar en euskaltel luego en la réplica podré comentarles algo más pero me parece que no debemos tampoco hacernos trampas al solitario una cosa es hacer un análisis saber si deviene importante y digamos posible esa

en la empresa euskaltel otra cosa será cómo con cuánto porcentaje y en qué plazo
y esperemos que sea para el bien de euskadi y para el bien de la ciudadanía vasca nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

porque señor casanova usted y yo debatimos este tema prácticamente cada trimestre y es que

intento dedicarme a hacerle entrar en razón sobre que el arraigo es importante pero no se hace

su propuesta de arraigo por cierto es asimétrica porque para unos sí muy interesado como es el caso que nos trae y para otros como kaiku pues parece que nada de nada porque como lo dejó claro el pasado día le parecía que no tenía excesivo sentido

la producción agraria no y eso me preocupa por qué no sé cómo de esa manera van a poder avanzar en la soberanía alimentaria pero bueno el arraigo de las empresas a euskadi es importante es muy importante pero en muchos casos depende por los menos de dos variables que la empresa se quiera quedar y que los demás la queramos aquí porque nos da un servicio el que sea

pero en este caso útil y le repetiré porque como estos debates se van reiterando le repetiré lo que le dije en abril sobre todo eso porque vuelve

ustedes se plantean el arraigo de las empresas a euskadi como una especie de concepción pastoril de crear organizaciones adaptadas al tamaño del país y en las que se arraigo va siempre acompañado de un incondicional amor

pero no en este mundo global a una empresa tecnológica como euskaltel

crecer en un ámbito en el que la competitividad es de alto voltaje crecer para ser competitiva para que los que aquí vivimos arraigados contratemos con ella no solo porque es de aquí sino porque nos ofrece precios y servicios competitivos el arraigo de una empresa no

con esa arraigada empresa y menos cuando la competencia es elevada y ataca por los cuatro costados salvo que nos propongan como el caso de la soberanía alimentaria esa de que los tomates de aquí los comemos de aquí y no dejamos que entren los de allí una especie de soberanía telefónica soberanía wifi soberanía televisiva es decir

cierro comillas acaba la autocita bien para ese arraigo aparte de otras operaciones como las ya realizadas por el consejo de administración de euskaltel de modificar los estatutos como ha señalado la señora corcuera de

poder ampliar la participación de euskadi a partir de algún fondo público

y sobre todo las instituciones porque su teléfono de parlamentario y el de todos los de aquí es de euskaltel no lo es

es una constatación de que los concursos públicos son una plasmación de la competitividad que no sabe de arraigos mientras tanto independientemente de que se pueda criticar alguna actuación en euskaltel

y ha sido un elemento determinante de su actividad desde el inicio de sus operaciones en enero del noventa y ocho ese arraigo

y se ha manifestado históricamente desde el punto de vista societario porque su origen es el de una empresa hecha por las entidades vascas como todos sabemos para dar servicios

aunque el tiempo demostró que había que dar más que esos servicios si se quería ser una empresa viable

en un mundo amplio global y enormemente competitivo

que no fuera competitiva y que perdiera dinero podría ser pero creo que no es lo que queremos

el objetivo de no olvidar su origen y su vocación con la salida a bolsa en julio del dos mil quince se aprueba una modificación de los estatutos para garantizar el arraigo se definen los elementos de arraigo y se exige un porcentaje que en este caso es excepcionalmente alto para intentar modificar esos elementos de arraigo

objeto cambio de marca efectiva administración dirección

en euskadi esos son los elementos de arraigo la mayoría excepcional mínima para modificar lo del setenta y cinco por ciento luego un veinticinco por ciento

diferentes fondos de gestión gestionados por la propia kutxabank fondos vascos de pensiones accionistas vascos suman prácticamente ese veinticinco por ciento necesario y algunos accionistas que suman el quince por ciento se han alineado totalmente

de kutxabank otra cosa es que un representante de zegona que tiene un uno por ciento diga en londres que van a vender la red para obtener fondos y expandirse

y plantear una repetición del debate poco después después digo no antes

hace unas declaraciones en euskadi y dice que comillas hoy por hoy euskaltel no se plantea la venta de su red y punto no hay debate de momento pero no ustedes se han quedado con la primera declaración y vuelta la burra al trigo

se han hecho diferentes operaciones desde la fundación de euskaltel y podemos

seguir discutiendo sobre la oportunidad de cada una de ellas y sobre quién actuó bien y quién lo hizo mal podemos seguir

las omisiones de otros o el mediopensionismo ideológico de los de más allá

la cuestión es que estamos donde estamos y toca mirar hacia delante podemos seguir señalando

y pueden seguir señalando que se hicieron operaciones erróneas pero eso no va a evitar que estemos donde estamos

podamos avanzar juntos hacia el futuro que es lo que hay el futuro es lo que hay

entre e insistiré siempre se encuentra la propiedad de la red de telecomunicaciones en euskadi por cierto una red que por mucho que se venda de euskadi no se puede ir en euskadi se va a quedar esa no se puede llevar nadie

sea quien sea su dueño incluso y se lo dijo

colabora con intensidad con el gobierno vasco en el desarrollo de digitalización en entorno rurales ya se ha dicho el desarrollo conjunto con el gobierno con proyectos de emprendimiento y relación con las telecomunicaciones es decir hoy el capital social

que sabe que sus orígenes y muchos de sus objetivos siguen estando en euskadi

que para ganar confianza y asegurar más si cabe que la empresa euskaltel es de euskadi ahora intentemos

le pedimos al gobierno que haga un esfuerzo para que a través de un fondo público compre participaciones de euskaltel y pueda incluso llegar a sentarse en el consejo de administración y colaborar con otras entidades propietarias de la empresa para que el arraigo quede si cabe más garantizado todavía ir más allá como propone

en su propuesta pidiendo que la empresa se alinee con objetivos y políticas públicas en los retos de digitalización

en el ámbito audiovisual y más aspectos que forman parte del ámbito de actuación estratégica de una empresa no parece que sea un asunto propio de este parlamento

este parlamento no es para nada la junta general de accionistas de euskaltel

a participar del accionariado cómo debe hacer sus actuaciones de mercados o sus actuaciones estratégicas

algún día llegará pero no sé en principio no se nos ocurre pedirle a kaiku que haya yogures de txakoli porque es un producto más del país en vez de los de coco que vende

con el perfil del txindoki porque eso son cosas que en cualquier caso decidirá

miren insisto se han tomado decisiones que para unos son las correctas

y el futuro que nosotros creemos que es lo que importa

señor hernández yo no corro ni la behobia san sebastián ni siquiera se me ha ocurrido correr un fin de semana la antzuola bergara que sería cuesta abajo cada uno los fines de semana

pero en este caso creo que ahora toca avanzar juntos intentar no volver a repetir este debate el trimestre que viene y empezar a avanzar juntos considerando la nueva situación accionarial real

y siempre respetando que es una empresa que tiene que tomar sus propias decisiones por eso

nosotros los grupos parlamentarios socialista y nacionalista y les invitamos a los demás a sumarse lo que le pedimos al gobierno es que de verdad haga un esfuerzo en entrar en el accionariado y así poder garantizar aún más el arraigo de la empresa en euskadi ni más

con su permiso yo me voy a sumar a la condena del señor hernández al golpe de estado que padecen los venezolanos hace muchos años

porque si la preocupación era la red de fibra óptica no veo que ninguno de los dos grupos

el proponente bildu o elkarrekin podemos plantee que si se vende que el gobierno vasco compre la red de fibra óptica

por lo tanto parece que el problema de la red de fibra óptica no es el problema si es que ese fuera de verdad el problema que como ya se ha dicho sea el propietario quien sea va a seguir donde está nadie se la va a llevar fuera como la red gallega va a seguir en galicia la asturiana va a seguir en asturias

y la catalana estará en cataluña tampoco se entiende muy bien

un punto y ustedes están preocupadísimos tiene un punto más que kutxabank

que el gobierno vasco compre euskaltel no que compre la red de fibra óptica en su caso si se vende que podría ser discutible o no

ninguno de los dos nos dice cuánto nos va a costar comprar euskaltel no no sí sí claro claro porque es fácil saberlo cotiza en bolsa

yo acabo de mirar a ver a cuánto estaba antes de subir aquí está

por lo menos en el último año de mayor valoración eso supone

para tener el cincuenta por ciento porque ustedes plantean que lo controle y que tenga capital mayoritario

en bolsa que mañana baja y ya

perdemos los vascos de esos ochocientos millónes que no sé de dónde iban a salir pero espero ver sus enmiendas a los presupuestos del gobierno vasco

se haga con el cincuenta por ciento del capital de euskaltel y luego cuando baje la bolsa ustedes explicarán a los vascos por qué hemos perdido cien millónes o doscientos en una empresa que por cierto

que en el año dos mil doce euskaltel tenía un pequeño problema tenía que pagar doscientos veinte millónes

por parte del gobierno vasco es que si no se llega a vender a lo mejor no estábamos hablando hoy de euskaltel verdad

para que entraran inversores y para poder pagar esa sanción esa multa y crecer

por eso nosotros votamos a favor de esa venta y nuestros votos no hacían falta pero votamos a favor de esa venta y por eso euskaltel está hoy donde está pero a mí esto me recuerda a aquel que vende la casa y cinco años después dice uy la casa vale mucho más

que nos la devuelvan al precio que vendimos y parece que algunos lamentan que euskaltel crezca

el operador de comunicaciones del norte de españa más importante

en cantabria empieza a estar qué les molesta que ya no es un chiringuito pequeño manejable para colocar amiguetes qué mala suerte tienen algunos a nosotros nos parece bien que no se puedan colocar amiguetes

no entendemos que si el problema era la red de fibra óptica no plantee oiga pues en el caso de que en su día si es que algún día lo venden

que tampoco sé por qué hace falta comprarla porque ya está donde está hace su función

o varios para operar porque los vascos qué ganamos con lo que ustedes plantean

en qué mejoramos la calidad de vida de los vascos con su propuesta en nada y del arraigo no voy a hablar más porque ya se lo han explicado bastantes veces y si no son conscientes de que euskaltel crece o se muere como todas las empresas o se hace más competitiva o desaparecerá

aunque eso sí la red seguirá en su sitio por donde va por todos los pueblos seguirá la red euskaltel a lo mejor no pero la red seguirá ahí

pero es evidente que euskaltel ha hecho lo que no están haciendo otras empresas vascas que es expandirse y crecer y ser competitivas

y en fin con la bolsa bajando pues hoy resulta que la acción de euskaltel sube un poquito

mejor que ayer por lo tanto algo estarán haciendo bien los gestores de euskaltel porque si vale más

pues parece que no lo están haciendo tan mal y desde luego nosotros lo que nos vamos a oponer siempre es que ustedes nos planteen bueno ya el señor hernández nos plantea la banca pública vasca también en el último párrafo de su propuesta nosotros nos vamos a oponer y lo dijimos desde el principio

o para entrar en empresas inviables o desde luego para montar chiringuitos me da igual

por apoyar a las empresas que las empresas crezcan que creen empleo si son tractoras como esta mejor y por supuesto el arraigo

nadie se lo plantea buscan excusas especialmente el señor casanova que no sé exactamente qué obcecación tiene con euskaltel

ya veo que el señor tellería y el señor damborena son de los que venderían el gorbea no porque total ahí va a seguir entonces lo podemos vender es como la red la red va a seguir aquí da igual que sea de unos de otros que se haga un uso u otro que se cobre un servicio u otro que se preste un servicio u otro

es verdad que el debate no es nuevo pero sí hay elementos nuevos hay elementos nuevos fundamentalmente dos primero que se ha verbalizado por parte del ceo de zegona lo que ya advertimos aquí en junio es decir que existía un

sobre la red de venta de la red de fibra óptica se ha verbalizado expresamente y segundo que se ha constituido ya formalmente aunque no de forma definitiva

más consistente de lo que inicialmente se planteaba esos dos elementos son los que nos han llevado a plantear aquí que se realice esta operación

nosotros lo que hemos propuesto es adquirir una participación suficiente para cambiar los equilibrios cambiar los equilibrios no es llevarse el cincuenta por ciento

estaríamos hablando de que ese veinticinco por ciento de bloqueo estaría gestionado no por etéreos fondos de inversiones o pequeños inversionistas sino por kutxabank y el gobierno vasco y por tanto ahí habría una garantía de que ese bloqueo se podría ejercitar y estamos hablando

y si además del gobierno vasco entra kutxabank reforzando su participación y entran las fundaciones bancarias ni siquiera esos noventa y seis millónes tendría que

porque es más interesante comprar el continente con el contenido dentro o comprar una parte

es más racional y sacamos un mejor aprovechamiento al dinero que efectivamente no nos sobra comprando una participación de euskaltel que nos permita incidir en el control de la totalidad de la empresa y también por tanto

que así a pelo pues no nos valdría para gran cosa he tratado de evitar repetirme

de forma exclusiva traído por euskal herria bildu y se seguirá dando si se tiene que dar

claro en el corto plazo pues nos puede producir hasta pereza volver a debatir de lo mismo pero si vemos que fruto de este debate hemos pasado de decir que euskaltel es una empresa privada en la que no podemos hacer absolutamente nada

a decir que al gobierno le pedimos que estudie en profundidad las posibilidad de entrar

que lo que le gustaría es que nos sentáramos en el consejo de administración como gobierno pues fíjese si el pequeño sacrificio de repetir los debates aquí cada tres meses ha dado sus frutos

no se ha materializado nada solo se ha esbozado una propuesta

nosotros evidentemente hemos saltado como un resorte

antes de que esa posibilidad se convierta en una realidad o por lo menos en una amenaza dentro de propio consejo de administración preferimos neutralizar ahora este debate

que por ahí no puede seguir antes de reaccionar cuando ya sea demasiado tarde y repito no quiero reiterar debates pero

no voy a dar lecciones a nadie pero sobre la evolución de euskaltel lo que iba a pasar y las predicciones que hizo cada cual sobre lo que iba a pasar pues podríamos hablar largo y tendido pero en resumen tal y como le dije a la consejera en la interpelación que le hice pues realmente ha ido pasando más o menos

que fuera a pasar y no ha pasado lo que el gobierno vasco y los que le apoyaban iban diciendo tampoco nos tranquiliza el cambio de presidencia en euskaltel

lo que sí tiene son acuerdos de gestión que le permiten la mayoría y sí lo que sí está haciendo zegona es marcar la línea porque una vez que zegona se ha hecho con el control mayoritario ha habido un cambio

de políticas y eso es evidente porque aparte del veintiuno por ciento cuanta con apoyos y ahí ha habido un cambio de presidente también no del consejero delegado no de quien manda de forma ejecutiva del presidente

que tampoco nos tranquiliza per se porque xabier iturbe estaba en la cúpula de euskaltel cuando euskaltel hizo la gamba que le llevó a tener que pagar

y xabier iturbe estaba en la cúpula de kutxa cuando kutxa hizo una serie de inversiones

en los balances y que llevaron precisamente al expresidente de su partido del país vasco a decir que la fusión de las cajas había sido un rescate encubierto de kutxa

nos tranquilizan los compromisos y nos tranquiliza que las cifras den y las cifras tienen que ser

minoría por lo menos de bloqueo o una minoría mayoritaria que no solo impida que se tomen determinadas decisiones perniciosas sino que sea capaz de traccionar al conjunto del consejo de administración

del país y mire señor tellería yo defiendo la presencia en kaiku me parece estupendamente usted no me entendió y digo no me entendió y no me expresé mal porque he vuelto a escuchar

no ha habido un incremento y que no se nos puede vender como incremento de la presencia y del arraigo una operación que no ha traído el incremento
a mí kaiku me parece respetabilísima y una empresa digna amaitzen joan de que se hagan inversiones

y volviendo a euskaltel como decía miremos al futuro podíamos recrearnos mucho en lo que cada uno dijo en el pasado porque yo creo que está bastante claro el tiempo a quién ha puesto a cada cual y en qué lugar

se saque la única conclusión lógica que es una entrada significativa y si no y si no pues efectivamente no tiren los apuntes no los dejen muy lejos porque si no

hacia delante bien toca mirar hacia delante pero nosotros desde luego no podemos mirar hacia delante sin el retrovisor sobre todo por una

es que nosotros lo que queremos es revertir algunos de los procesos y de las decisiones que se han tomado con respecto a la empresa euskaltel por lo tanto desde luego nosotros miramos hacia delante pero teniendo en cuenta lo que ha pasado porque precisamente nuestra mirada hacia delante tiene que ver directamente con todo ese proceso privatizador de la empresa euskaltel

la red va a estar aquí y que la empresa sigue siendo una empresa

el famoso arraigo si no va aparejado

sirva al interés general por ser un sector estratégico y por haber sido creada con recursos públicos en buena medida y si no sirve para que la totalidad de los empleos que dependen de esta empresa

directamente como para quienes trabajan a través de contratas sean empleos dignos

tampoco serviría no sería tal para nosotros la importancia del arraigo

tiene que ser esa porque podemos avanzar juntos sí pero si tenemos los mismos objetivos y esa es la parte

porque en estos momentos para nosotros las políticas de la empresa euskaltel lo que están trayendo respecto al empleo es eso además de determinadas pérdidas de puesto de trabajo en este momento creo que hay noventa en riesgo en la empresa cuyos trabajadores están aquí presentes

además propicia condiciones de trabajo que no son unas condiciones de trabajo dignas

si el futuro va a ser garantizar que la red de fibra óptica siga en manos de una empresa privada que no garantiza unas buenas condiciones de trabajo

pues para nosotros desde luego eso no es suficiente y nosotros lo dije otra vez tampoco estamos en contra de que la empresa

o que sea más o menos competitiva pero hay diferentes maneras de hacer eso

el crecimiento y la expansión de una empresa si es a costa de machacar a las y los trabajadores a nosotros desde luego no nos sirve no nos sirve el crecimiento del capital a costa de la clase trabajadora a nosotros no nos sirve porque pensamos que además hay alternativas que pueden equilibrar perfectamente la viabilidad y la competitividad

y más en sectores como estos con el mantenimiento de unas buenas condiciones de trabajo que además en nuestra opinión también son buenas para una empresa más competitiva aunque no sea a raíz

se hacen competitivas algunas empresas desgraciadamente nosotros

para nosotros la banca pública es importante y creemos que quedó demostrado en la última crisis la necesidad de contar con elementos financieros de este tipo

enmienda que ha presentado el partido nacionalista vasco y el partido socialista

tendremos que ver si tenemos los objetivos los mismos objetivos nosotros y en vista a las políticas que ustedes han realizado respecto a euskaltel hasta este momento desde luego creemos que no tenemos los mismos objetivos eskerrik asko

gracias presidenta vamos a ver

al menos por el tema de la melancolía pero sin ninguna melancolía pero sí es bueno

y conocer el pasado con todos sus detalles

no me reconozco como habiendo errado en este

sino porque nos conviene para lo que pueda ser en el futuro cómo superar también ciertas crisis porque euskaltel y la venta de euskaltel

de pagar aquellos doscientos veinte millónes sino porque el gobierno vasco

plena crisis económica plena crisis financiera plena crisis social ayuntamientos con una ley de sostenibilidad financiera que les impedía

que eusko alkartasuna y aralar pretendían que el gobierno vasco entonces fuese un operador de telecomunicación lo que iba en contra de la directiva europea

privada como si fuera una empresa pública en base a las reglas del mercado que imperaban y que imperan hoy en día y porque no se trataba de perder ningún patrimonio

no se regalaba patrimonio aquí nadie se inventó una valoración de euskaltel nadie ni el consejero

aquella propuesta aquello tenía informes económicos con nombres y apellidos y firmas y nadie se inventó ninguna valoración es más

que fuesen los ayuntamientos los que comprasen como si los ayuntamientos fuesen esas entidades solventes económicamente en el año dos mil doce

crisis económica en la que no se dejaba a los ayuntamientos endeudarse absolutamente nada euros y entonces oh cielos maravillosa propuesta que los ayuntamientos comprasen euskaltel para seguir con el control público

impedía tener ese control público que los representantes de eusko alkartasuna y de aralar

y la venta que sirvió para que pudiesen tener fondos y poder tener más accionistas y realmente pagar los doscientos veinte millónes que se debía por parte de euskaltel también supuso

no pudo obtener ni una reforma fiscal para aumentar los ingresos del año dos mil nueve al dos mil doce ni una

ya vamos dos entonces ninguna así que aquí nadie se forró nadie hizo valoraciones extrañas no se regaló ningún patrimonio y por lo tanto no podemos a veces decir cosas sin conocimiento de causa y yo se lo he puesto encima de la mesa el conocimiento

que se adquiera la parte mayoritaria de la empresa para echar a zegona

usted cree que con la participación si ese análisis que va a hacer en profundidad el gobierno le lleva a adquirir participaciones

pero si el compromiso está si realmente se está ampliando incluso la red

para llegar a núcleos rurales para estar colaborando entre el gobierno y euskaltel para las startups pero de qué estamos hablando

no miramos lo que no queremos ver en fin señor casanova luego ya claro el discurso este alarmista y catastrofista

es que no cuela porque si uno realmente tiene las pretensiones que usted quiere o pretende a través de su iniciativa yo no sé para qué vota a favor la enmienda porque es una enmienda que dice que el

oiga entre un tres y un cinco por ciento o hasta un veinte

tampoco es que dé mucho para que el gobierno compre esa mayoría y no se va a echar a zegona entonces en fin tengamos las cosas un poco claras yo entiendo y comparto la necesidad del gobierno de mantener y de reforzar posiciones

por ello estamos sosteniendo al gobierno por ello apoyaremos también los presupuestos porque no se olvide señor casanova que si no salen los presupuestos no sale la disposición adicional

tener ese marco legal de amparo así que en fin en eso estaremos porque no podemos tampoco cerrar los ojos ante el hecho

de ser el fondo económico que permita esa participación si no sale la disposición adicional que lleva el proyecto de ley de presupuestos para el año dos mil veinte no tendremos el uno de enero

yo no le llego al liberalismo del señor damborenea ni a la suela del zapato

pero cuando hablo de vender y de que aunque se venda que queda

de hecho cantidad de terrenos del gorbea cada semana se venden y se compran

y por tanto lo puede hacer uno u otro pero

o uno de zeanuri seguirá estando ahí por tanto

no es exactamente no es mimético mientras no nos vendamos el alma el resto en principio podemos trabajarlo

euskaltel es una empresa cotizada es una empresa

no hablemos de unidades de acción o de otro tipo de cosas

me alegra que digan que están de acuerdo

nosotros en aquel momento la enmienda que presentamos y que es la que se aprobó

y luego decía el parlamento vasco insta al gobierno a desarrollar una política de inversiones significativa y sostenible en las empresas estratégicas para garantizar su vinculación al territorio

dé este paso pero no se sorprendan por lo que estamos diciendo parece como que nos hemos caído

veníamos diciéndolo y ustedes aprobaron esta propuesta nuestra

iba a decir que nos alegraba la presencia de iturbe en la presidencia que era un paso más pero no lo voy a decir porque me van a decir que es un florero que el presidente es un florero como lo ha dicho otras veces y

y he pensado voy a hablar con iturbe y le voy a decir que no se preocupe que en veinte años

porque son un poco retardados en la reacción ante las cosas y en cualquier caso

hay que mirar hacia adelante usted puede poner el retrovisor y todo el mundo puede poner el retrovisor y volver a analizar y reanalizar

pero eso en el fondo reconózcanme entorpece muchas veces el debate si nos ponemos en una cosita pequeña de acuerdo en una cosita pequeña y estamos dispuestos a avanzar avancemos en esa cosa pequeña y luego en privado pues nos ponen a parir por lo que hemos hecho o lo que creen que hemos hecho o hemos dejado de hacer pero

seguramente pervertimos el debate del pequeño punto de encuentro que tenemos para avanzar y en cualquier caso sí le aviso el modelo

es simplemente volver a constatarlo el modelo de control público de una empresa por qué euskaltel sí y talleres

por la garantía de empleo por determinados aspectos pero no es así y por qué euskaltel es estratégica y talleres martínez no empezamos a analizar la estrategia

habrá que dejar también un poco que el mercado y la realidad fluya aunque

y creo que en este caso si avanzamos

intentar amachamartillar el arraigo de una empresa como euskaltel en euskadi pues ya hemos avanzado muchas gracias eskerrik asko

cuando en el dos mil doce vendió la red ganó dinero que le vino muy bien al gobierno vasco

porque le daba valor y entraron nuevos inversores que pusieron dinero y por eso la empresa siguió adelante y por eso estamos hablando hoy de esa empresa el señor casanova nos dice el

muchas muchas veces y ahí sigue en el mismo sitio sin moverse y dice no he traído este debate porque la novedad es

una especie de proyecto de fondo porque de momento lo que nos han traído es una cuenta contable en el instituto vasco de finanzas y están sin aclarar las condiciones en las que se va entrar o cómo se va a invertir o para qué se va a invertir o la cuantía que se va a invertir en los

el discurso porque dice no no hemos planteado que se compra sí sí han planteado si usted nos dice literalmente

uno si usted quiere eso es la mayoría del control de la empresa y eso hoy son ochocientos millónes pero el viernes eran setecientos

no es buena idea instarle a un gobierno en un parlamento a que compre acciones en bolsa porque puede hacer que suban porque claro si sale que compre el gobierno vasco las acciones en bolsa pues a lo mejor coge y suben y entonces todavía nos sale peor

que es lo mismo que plantea elkarrekin podemos pero nos dice proceso de retorno al control público de la red y de la empresa

control público es más del cincuenta por ciento los dos han planteado exactamente lo mismo en cualquier caso nosotros señor hernández

nos alegramos mucho de que los derechos laborales que tienen los trabajadores

en corea del norte en cuba o en venezuela que son sus referentes

se debe en la mayoría de las ocasiones a que las mujeres trabajamos en sectores peor pagados y menos horas por ser las que más contratos parciales tienen de hecho una de cada cuatro mujeres trabajadoras vascas el veinticinco por ciento tiene un empleo a jornada parcial un porcentaje que cae hasta el siete por ciento

es decir la parcialidad es altamente femenina y no siempre voluntaria y esto afecta de forma directa a las diferencias salariales las mujeres

económicamente y además una menor jornada laboral dado que las mujeres tienen mayores de parcialidad y de temporalidad en sus contratos de trabajo producto de esta situación en los últimos años estamos viendo cómo se suceden conflictos laborales

sectores en los que son las mujeres las que tienen un empleo generalmente parcial muchas veces precario y habitualmente muy poco valorado sectores en los que hay un alto número de conflictos laborales como son las residencias de bizkaia las residencias de gipuzkoa la

la limpieza en comisarías y juzgados el servicio de ayuda a domicilio de muchísimos municipios vascos la limpieza del ayuntamiento de elorrio y de otros muchos consistorios

y sin olvidarnos de la situación injustificable y anacrónica de las trabajadoras de hogar de las que hablaremos hoy en este pleno pero será más tarde

a la idea de a lo que me estoy refiriendo y desde elkarrekin podemos desde nuestro grupo parlamentario

son sectores en los que se muestra claramente la foto de la situación en el empleo que viven muchas de las mujeres de este país sufren la brecha salarial tienen mayor temporalidad

nichos de empleo menos valorados y son generalmente indispensables para el sostenimiento de la vida por todo ello es tan importante la iniciativa que hoy estamos presentando una propuesta donde el centro del debate sea abordar un plan de choque que erradique la precariedad en el sector de los cuidados

que son los empleos indispensables para el sostenimiento de la vida aquellos menos valorados en el mercado y generalmente aquellos que acumulan por ser prestados en un sector

un factor mayor de vulnerabilidad y de precariedad y esto claro es un problema de la sociedad patriarcal en su conjunto y en otros lugares pero qué es lo que pasa concretamente en euskadi aquí en casa los sectores de cuidados en concreto mayoritariamente ocupados por mujeres

y en concreto aquellos que dependen de las propias instituciones públicas de forma directa o indirecta se sitúan con un nivel de precarización importante porque no

sostenible y porque tienen impacto en la calidad de vida de las trabajadoras pero también

y en el de sus familias y por tanto en la calidad de vida y en el bienestar del conjunto de la ciudadanía en euskadi

están haciendo un gran esfuerzo por una mejora de sus condiciones laborales por la calidad de los servicios y por darle centralidad a unas tareas imprescindibles

y es por lo tanto nuestra responsabilidad y sobre todo nuestra obligación hacernos eco en las instituciones donde tenemos representación pública y es urgente es urgente ser capaces de dar respuesta desde una institución como el parlamento afrontar con visión integral y estratégica esta situación porque es una situación que tiene que ver con la calidad del empleo

de las vidas y esto esto es bien común pero de verdad más allá de titulares y de cuñas publicitarias estamos hablando de bien común

se ha generado por décadas de ese menor reconocimiento simbólico y material de las tareas feminizadas y desde nuestro grupo parlamentario queremos que euskadi

pongan las vidas en el centro y de que esas vidas sean sostenibles y sean motor del bienestar del conjunto de la sociedad y por eso ponemos y traemos esta proposición

es indispensable pararse a pensar y proponer soluciones estructurales a problemas estructurales soluciones concretas a problemas concretos es indispensable

con el firme propósito de que los empleos de las mujeres tengan el mismo valor y tengan el mismo espacio en el lugar central de la agenda y eso hay que hacerlo con una mirada

desde donde más se ha analizado y profundizado en las propuestas realmente transformadoras que superan la simple distribución de tareas entre mujeres

conflictos laborales en los sectores altamente feminizados esta conflictividad laboral responde entre otros motivos a una situación que se ha generado durante décadas por el menor reconocimiento simbólico y material de los trabajos de cuidados y en general de todas las tareas que están altamente feminizadas la fotografía de la realidad es muy clara como ya ha quedado patente en este parlamento

son los menos valorados los sectores de cuidados están altamente precarizados no son considerados un eje imprescindible para el desarrollo sostenible de euskadi

de toda la ciudadanía en euskadi hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo las trabajadoras por una mejora en sus condiciones laborales por dotar

como son los cuidados que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida digna es por lo tanto urgente afrontar con visión integral y estratégica esta situación de numerosas familias con dificultades para responder a las necesidades de cuidado y los múltiples conflictos laborales que son síntoma

amplia que impacta en miles de trabajadoras y en toda la ciudadanía queremos como les digo avanzar hacia una sociedad en la que las instituciones

y las políticas pongan las vidas en el centro y se orienten a la sostenibilidad para ello

tenga por fin el reconocimiento social y material que le corresponde un sector con gran potencial para ser uno de los motores imprescindibles de una economía que ponga la vida y el bienestar de las personas en el centro y por todo ello hemos presentado

queremos que el parlamento reconozca las causas de los conflictos que existen actualmente y que las instituciones vascas reconozcan y ejerzan su papel en estas situaciones porque tienen responsabilidad porque se puede

en estos conflictos queremos por otro lado un plan de choque contra la precariedad y la brecha salarial en el sector de los cuidados porque la estrategia está bien la estrategia

está bien pero no es suficiente por sí sola para que se cubra el actual déficit y la situación

porque es indispensable que se genere empleo de calidad en el sector y para que se desarrolle un sector ninguneado por las políticas de desarrollo económico que hace el gobierno nunca hemos escuchado a la señora tapia una sola palabra sobre este sector y este sector es uno que no se deslocaliza y sobre todo es uno que incide directamente sobre la calidad de la vida de la gente nosotras

lo que proponen el resto de grupos son cuestiones que compartimos por eso firmamos la moción que dio origen al acuerdo

en el tintero para que saliera adelante con respecto a la enmienda presentada por los grupos que apoyan al gobierno nosotros compartimos por supuesto

y consideramos que es un paso importante pero evidentemente no puede ser el único y también compartimos

no obstante no podemos ni queremos quedarnos en lo que ya hay porque eso no es impulsar al gobierno ni cambia lo que no funciona lo que hay que hacer es mejorar lo que hay que hacer es

concretas plan de choque eso es lo que nosotras proponemos hoy y por otro lado estamos de acuerdo con las medidas que propone la señora kortajarena y de hecho las hemos contemplado en la enmienda pero

la realidad es que no tienen que ver con lo que nosotras proponíamos hoy concretamente

deslavan demasiado el objetivo que nosotras hoy planteamos lo que no quita para que estemos completamente de acuerdo con lo que usted

en definitiva hoy nosotras hemos venido a hablar del sector de los cuidados de la precariedad que sufren muchas mujeres en euskadi

concretas que planteamos para a través de un plan de choque poner fin

la vida digna y de calidad en el centro de las políticas y la vida digna y de calidad para todas eskerrik asko eskerrik asko

sustatzea cuando vimos la iniciativa presentada por podemos consideramos más oportuno

recientemente habíamos debatido sobre esta cuestión y que para nosotros sin duda es una prioridad hemos hablado mucho de cuidados de las personas cuidadoras

hemos hablado de residencias también hemos instado recientemente al gobierno vasco a revisar el decreto de centros residenciales

en relación al desarrollo de la ley de servicios sociales cuando el año pasado se cumplieron diez años de su vigencia y el balance

las expectativas que se fijaban en la propia ley pero nosotros viendo que había un acuerdo recientemente aprobado por unanimidad en este parlamento en relación a los cuidados nos parecía más importante recuperar dicho

independientemente luego también de los aspectos que podrían contemplar los diferentes grupos en sus enmiendas de transacción que hemos analizado

horretan ez dakit gainera no sabemos exactamente también el grado de cumplimiento de la moción

muy concretos en relación a este punto en esta moción que nosotros hemos considerado conveniente recuperar

se hablaba de que el gobierno vasco tenía que realizar o instábamos a que el gobierno vasco realizara campañas de sensibilización para el reconocimiento del valor social de los cuidados con una necesidad de visibilizar las tareas de los cuidados hablábamos también de que en el parlamento vasco se elaborará un informe sobre cómo promover la sostenibilidad de la vida y luego poníamos deberes concretos

poníamos deberes concretos al gobierno en relación a realizar un análisis del modelo actual de los cuidados situación actual evaluación de las políticas actuales que se estaban implementando y medidas

de apoyo a las personas cuidadoras como decía sí que es cierto que hay algunos aspectos y en ese sentido nos hubiera gustado un acuerdo más amplio de la enmienda presentada

y además recientemente varios grupos en esta cámara aprobamos

de los centros residenciales quedan también decretos pendientes y en ese sentido sí que coincidimos donde no tenemos una coincidencia es en el otro punto

presentada y también con la enmienda presentada inicialmente por el partido nacionalista vasco pues no tenemos tampoco en principio podíamos tener problema pero creemos que también se quedaba

un poco corta y que quizás era demasiado general

creemos que hay que avanzar en varias cuestiones en el reconocimiento

en cuenta que es un sector claramente feminizado el impacto también que tiene en el núcleo familiar

en el debate que se sustanció el pasado siete de marzo los cuidados son tareas duras

además un impagable valor social y estas cosas obviamente tienen que ponerse encima de la mesa hay que poner en marcha y en este sentido sé que el gobierno está trabajando y no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo pero también creemos que hay que hacer una apuesta más

incidiremos en esta cuestión en todo lo que tiene que ver con la conciliación y con la disminución

salarial cuestión además que incide claramente en este sector en el sector de los cuidados en un sector como digo claramente feminizado

enmienda de totalidad es más completa porque hace referencia a un acuerdo que ponía deberes concretos al gobierno vasco y en ese sentido gure

que apuesta por la mercantilización de los cuidados lo dije y lo repito en otra discusión que tuvimos sobre el tema

un negocio rentable sino poner a las personas en el centro poner su vida

porque cuando los gobiernos funcionan como un agente económico como un agente económico más pues los servicios públicos y sobre todo las mujeres tenemos mucho que perder

pero señoras y señores yo les voy a hacer hoy una pregunta ustedes quieren que cuando sean mayores les cuide un robot o una máquina pues

qué pretenden cómo pretenden dar la vuelta a esta situación hori dena emakumeen prekarizazioaren bizkar egitearen jarraitzea pentsatzen duzue

indartzen ari den ideia bat y es la que economistas sociales como joseba permach denominan como el silencio de los cuidados

en la que se van a necesitar cuidados las ocupaciones relacionadas con todo ello no se ven y que no

pues no menciona para nada en sus ejercicios prospectivos los cuidados se está escondiendo uno de los elementos uno de los más importantes empleos del futuro

al servicio de las personas sino también por el número de personas que van a ser atendidas

se prestigia tanto la digitalización y no el cuidado de las personas cómo afecta

esto al reconocimiento de estos trabajos sus sueldos y sus condiciones laborales qué efecto tiene todo esto en la brecha salarial seguramente todo esto se esconde

porque eso tiene que ver con que eso nos permite tirar sueldos y establecer condiciones laborales que no son aceptables nosotras no vamos a optar por eso y vamos a visibilizar esos trabajos de cuidados

que nos permitan construir nuevas realidades y realidades dignas

que la externalización de estos servicios también genera otra serie de situaciones de precarización

pero no hay alternativas para dar respuesta a ese tipo de situaciones incluso en casos de externalización

ya nos marcan la necesidad de repasar

y de utilizar la contratación pública para fines y objetivos políticos para poder conseguir esos objetivos comunes esos objetivos sociales

por eso la aplicación de cláusulas sociales en la contratación adquiere especial relevancia

de solventar la brecha salarial cuando se quiere estar en ese top

brecha salarial o cuando se quiere abordar situaciones de igualdad

por el empleo de calidad por eso nosotras sí entendíamos que

estaban todas esas decisiones políticas que vamos a adoptando

en todo caso como decía al principio compartimos con los proponentes la filosofía y el planteamiento

y compartimos necesidad y urgencia de poner las vidas y los cuidados en el centro por eso nosotras nos vamos a mantener también en nuestra iniciativa porque consideramos que es importante y porque hay una dejación de funciones de este gobierno en este sentido mayúsculo pero también votaremos a favor de la iniciativa presentada

como hace quince días en el pleno del treinta y uno de octubre sobre precariedad laboral y brecha salarial aunque en esta ocasión

pidiendo la elaboración de un plan de choque contra la precariedad laboral exclusivamente para el sector de los cuidados

de la ciudadanía vasca en esa ocasión se solicitaba en su iniciativa por el grupo elkarrekin podemos que se elaborara un plan de choque donde se aborde la precariedad laboral la temporalidad y la brecha salarial

sobre brecha salarial ya existe porque el gobierno vasco aprobó la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial en euskadi

del dos mil dieciocho donde se pone en marcha una estrategia para reducir la brecha salarial a corto plazo en el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte y dar respuesta al requerimiento de este parlamento vasco que se instó

este plan de acción es además un compromiso del programa de gobierno para la

un compromiso social indispensable por la igualdad entre mujeres y hombres y de manera especial en el ámbito

y un compromiso adquirido a su vez por parte del departamento de trabajo y justicia con agentes económicos y sociales en este plan operativo para reducir

les indicaba que se incluye ya un diagnóstico de situación actual y evolución reciente de la brecha salarial en la comunidad autónoma de euskadi y las recomendaciones recogidas a través del proceso

económicos y de la ciudadanía en general personas expertas del ámbito académicos asociaciones de mujeres organismos instituciones

como finalidad el poner a euskadi hasta el año dos mil treinta

que se sitúe entre los cinco países europeos con menos brecha salarial el plan operativo contiene una previsión de recursos económicos de doscientos ochenta y tres millónes a distribuir en el horizonte dos mil diecinueve dos mil veinte en la iniciativa de hoy se pide previsión de recursos pero es que esto ya está hecho el contenido de la estrategia y el plan operativo se desarrollará además en coordinación con los distintos departamentos del gobierno vasco porque tiene un carácter

interinstitucional y con la mesa de diálogo social

hay que seguir dando pasos para luchar contra la precariedad laboral contra la brecha salarial y social y en el desarrollo de nuestro sistema de servicios sociales lo hemos hecho los últimos años pero ya tenemos mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que no se necesita elaborar un nuevo plan de choque sino seguir aplicando y sacando resultados aprobado hace un año en el pleno del treinta y uno de octubre no se aprobó la necesidad de realizar este plan de choque

que se elaborara de nuevo hoy nos traen otra vez la misma petición solo quince días más tarde pero como dije en el pleno anterior pidiendo que ahora se elabore

y nosotros consideramos que no es necesario pero además tampoco es la primera vez que se realiza esta petición porque el siete de marzo del dos mil diecinueve debatimos una moción referente también

de eliminar la brecha salarial en las administraciones vascas y en especial

que se encuentran en huelga en aquella ocasión les indiqué que mi grupo parlamentario no estaba de acuerdo con la moción planteada por el grupo elkarrekin podemos

a nivel de administraciones y gobiernos locales forales y autonómicos se llevan a cabo actuaciones dirigidas a cercenar y vulnerar el ejercicio del derecho de huelga

y en esta iniciativa vuelven a repetir exactamente lo mismo y eso no es correcto porque las instituciones vascas

laborales si no se pide expresamente la mediación por las partes la resolución de conflictos debe darse en el ámbito de la negociación colectiva entre las partes

afectados y además en su punto uno implicaría la necesidad de publificación de todos estos servicios en esa iniciativa se mezclaba también exactamente igual que en la de hoy como en que la petición de un salario mínimo de mil doscientos euros mensuales por catorce pagas

diferencias retributivas tengan la categoría profesional que tenga el trabajador

y eso porque mezclan cuestiones que no arreglan per se la brecha salarial actualmente existente y hace

de nuevo como nos tienen acostumbrados repiten una iniciativa prácticamente idéntica el siete de marzo porque aunque no recogían literalmente que se refería al sector de los cuidados sí hacía referencia a que se refería a sectores

en huelga solo cambia que ahora lo que piden es que se elabore este subplan de choque y a nivel nacional el uno de marzo del dos mil diecinueve el gobierno de españa ha aprobado el real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades

y la ocupación cuyo objetivo es eliminar la brecha salarial y garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad

a nivel autonómico y estatal que se han adoptado en la lucha contra la brecha salarial y demuestra el compromiso del gobierno vasco y el compromiso del gobierno

contra la brecha salarial estamos en la buena dirección y además la lucha contra la brecha salarial se está acometiendo desde una perspectiva interdepartamental por nuestra parte no consideramos que tiene que haber un plan de choque especial del global existente en la actualidad y aprobado ya por el gobierno en los tres subpuntos vuelve a mezclar la publificación la negociación colectiva

o asuntos sobre los que el departamento de trabajo y justicia no puede porque las modificaciones en estas materias tienen que hacerse a través del gobierno de españa es por ello por lo que nosotros vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad

en la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial

y el cual se va a desarrollar entre diferentes departamentos del gobierno vasco de una forma interdepartamental y con la mesa de diálogo social de euskadi y también se insta

la estrategia de apoyo a personas cuidadoras

que hemos intentado llegar a una enmienda transaccional con el popular la señora garrido ha indicado en su intervención que está de acuerdo con lo que nosotros planteábamos dentro de nuestra enmienda a la totalidad pero quería defender la suya nosotros le hemos propuesto hacer una enmienda a la totalidad incluyendo su punto

no ha querido yo lo siento porque entonces pudiera haber salido aprobado dentro del pleno de hoy esta enmienda

nosotros vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad

la que consideramos más correcta este es el camino a seguir y es el que nosotros vamos a defender nada más y muchas gracias eskerrik asko

todos los grupos coincidimos en que las mujeres son en su mayoría las que se encargan de los cuidados dentro y fuera del hogar unos cuidados necesarios que todas y todos hemos necesitado y necesitaremos en las diferentes etapas de nuestra vida eso ha hecho que esos cuidados

altamente precarizado que perpetúa la brecha salarial y que en muchas ocasiones se lleva a cabo sin ningún tipo de remuneración egoera horri buelta emateko bide luzea daukagu oraindik

el séptimo plan de igualdad de mujeres y hombres en el que propone situar la vida en el centro y dotar de visibilidad y de valor a los cuidados

el departamento de empleo y políticas sociales lleva tiempo desarrollando medidas que posibilitan la corresponsabilidad como el reciente decreto con el que los progenitores no gestantes de euskadi pueden disfrutar de un permiso retribuido de hasta dieciséis semanas o la reducción de jornadas y excedencias para el cuidado de hijos

y por ese camino seguirá trabajando porque de hecho el departamento de empleo y políticas sociales ha incrementado como hemos sabido en los presupuestos presentados esta misma semana

el gobierno vasco está elaborando un estudio sobre personas cuidadoras en euskadi que sirve para desarrollar la estrategia de personas cuidadoras en la que ya está trabajando y que traerá a este parlamento en la moción aprobada en marzo se instaba a presentarla antes de final de este año bueno pues todavía estamos en plazo verdad señora garrido

no tengo el ánimo de repetirme sobre las medidas que se están llevando a cabo porque no es un debate nuevo pero veo la necesidad de indicarlas porque aquí parece que no se está haciendo nada y resulta que se está haciendo mucho y desde hace mucho tiempo porque el ejecutivo en su programa de legislatura ya recoge el compromiso de combatir la discriminación salarial e impulsar la igualdad efectiva entre mujeres y hombre en el entorno laboral porque supone una prioridad y ese sentido estamos viendo cómo se están desarrollando diferentes iniciativas

fruto de esos compromisos surgió la estrategia y el plan operativo de acción para reducir la brecha salarial en euskadi que nosotros junto a los socialistas vascos defendemos en nuestra enmienda es una estrategia que como saben tiene como objetivo situar

salarial en dos mil treinta los retos que se presentan para esa fecha dos mil treinta son eliminar la discriminación salarial directa reducir la brecha salarial indirecta reducir la segregación ocupacional profundizar en una educación desde la igualdad y para la igualdad apoyar una nueva organización social de los cuidados

en ese objetivo al conjunto de la sociedad vasca por lo tanto vamos a dejar que continúe avanzando vamos a dar tiempo vamos a ver cómo evoluciona esos retos veremos en el dos mil treinta donde nos sitúan y además ya estamos viendo

vamos a darle insisto tiempo cuenta además con sesenta medidas que son medidas concretas y como ha dicho la señora sánchez con doscientos ochenta

que van a generar y que ya están generando cambios necesarios e importantes cambios en la cultura en la corresponsabilidad y eso efectivamente no se hace de la noche a la mañana en eso estamos de acuerdo pero por eso se fijan unos plazos realistas y concretos

por supuesto que sí pero se van haciendo cosas se van dando pasos y eso también hay que reconocerlo y no por proponer nuevos planes de choque

que aceptarlos o cambiar los que ya tenemos además del plan de

incluye la perspectiva de género para luchar contra la discriminación laboral en la inspección de trabajo y en la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones

también ha llevado a cabo un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las personas empleadas del hogar y la guía de prevención de riesgos laborales para ellas

de igualdad retributiva que también conocen bien y que lucha contra el fraude en materia de jornadas de trabajo contrataciones temporales y tiempo parcial cuestiones que en general afectan más a mujeres

de contratación pública además existe también un grupo específico dentro de la mesa de diálogo social

para cambiar esa situación en ese espacio para tomar medidas que favorezcan a la ciudadanía y que

porque además se trata de una mesa en la que están representadas tanto las instituciones como los agentes

insisto que son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo pero demos tiempo para que puedan ser efectivas

más aún cuando se requiere de un cambio cultural y de una implicación por parte de toda la sociedad y en ese sentido nosotras

la enmienda que hemos presentado junto a los socialistas vascos porque no apoyamos

no podemos compartir la afirmación que hace en el punto uno nosotros creemos en el modelo mixto y además muchos de ellos están gestionados

por lo tanto no podemos compartir esa afirmación y el punto dos cuando

adopten medidas desde una visión global y estratégica incorporando perspectivas de género reconociendo el valor social de los cuidados

que como ya le he dicho cuenta con sesenta medidas concretas que tratan de abordar esta problemática y que creemos que

que se realice ese plan de choque y bueno ya le digo que nosotros insistimos en que existe esa estrategia que es muy completa y que está

y tiene unos retos muy importantes y tiene una perspectiva además interdepartamental por lo tanto creo que vamos a darle la oportunidad

claro ustedes mezclan aquí unos puntos dentro del apartado tres en el que como le ha dicho la señora gloria pues se meten unas medidas que son cuestiones que se tratan en la negociación

por tanto tampoco las vamos a apoyar y luego en el punto cuatro sobre dotar de recursos el plan de choque insisto me remito a la estrategia y al plan que ya tenemos que además sí que trata además de esas medidas concretas con un presupuesto claro y concreto para llevarlas a cabo así por eso nuestro grupo bueno pues vamos a apoyar nuestra enmienda porque creemos que sí que aborda las medidas

en el sector de los cuidados porque existen planes existen acciones existen medidas

y este gobierno tienen una prioridad y un objetivo claro y va por el buen camino en la lucha contra la desigualdad eskerrik asko eskerrik asko

señora garrido señora sánchez y señora molina que nosotras hemos venido hoy a debatir y poner soluciones

es muy clara y muy concreta nuestra propuesta hay un problema de invisibilidad del sector de los cuidados existen diversos conflictos laborales

y ustedes lo que han hecho tanto con sus enmiendas como con parte de lo que han dicho en sus intervenciones es recordarnos lo que ya sabemos es

porque las dos enmiendas parten de acuerdos o de iniciativas presentadas por elkarrekin podemos en esta cámara y yo ya les agradezco que me recuerden el trabajo

hemos hecho en esta cámara pero es que la enmienda de la señora garrido hace mención a la moción sobre cuidados sociedad

que es una iniciativa presentada por mi compañera eukene arana y en la estrategia señora molina para reducir la brecha salarial del gobierno de la que usted habla que usted enumera y que usted nos ha leído

fue aprobada en noviembre de dos mil dieciocho y viene impulsada por varias iniciativas y por una de ellas de febrero de dos mil dieciocho sobre la desigualdad de género en el mercado laboral donde en el primer punto

de elkarrekin podemos entonces no tengo muy claro si es que ustedes son de podemos y no lo saben o es que en realidad no les interesa tomar medidas concretas creo que es esta segunda parte en cualquier caso háganselo mirar porque me encuentro ante una iniciativa donde me están enmendando ustedes con iniciativas que nosotras habíamos presentado

cuando la parte empresarial el propio cliente afectado es la administración pública por supuesto que tienen responsabilidad

pero es que les estoy hablando de la realidad los planes de choque son para solucionar la realidad contemos la realidad a las decenas de mujeres a los cientos de mujeres que trabajan en residencias con unas condiciones laborales

contémosles o leámosles todas las acciones del plan de la estrategia contra la brecha salarial

vamos a publicar que estamos a mediados de noviembre vamos a publicar

es que para eso estamos aquí no para leernos el trabajo o los acuerdos que hemos hecho

nos sirve a todos para recordar cuál es el trabajo de mi grupo parlamentario en esta cámara pero creo que

muy triste porque en sus intervenciones he oído palabras como es una prioridad compartimos el diagnóstico hay un reconocimiento ninguna va a apoyar yo no sé si ustedes como no tienen muy claro todavía quieren pensarse si votar a favor de nuestra propuesta porque realmente lo que están haciendo es enmendar con propuestas nuestras con trabajo que ya hemos hecho y encima les importa más sacar pecho a ver quién ha venido aquí a hablar o quién ha llegado a acordar lo que hay que hacer es dar soluciones a todas las mujeres que están trabajando en esas condiciones que no son dignas lo que no podemos

lo que tenemos que hacer es tomar medidas concretas y sí que hay que hacer un plan de choque concreto lo que no podemos hacer es coger y hablar de muchísimas cosas lo que hay que hacer es empezar por sectores a tomar medidas concretas y de eso va o así entiendo yo la política

no para leernos entre nosotras todas las estrategias acciones planes que están muy bien pero que se quedan sobre el papel que en el día a día

no están y lo que le estamos diciendo es que dentro de esa estrategia que claro que está bien y puede ser una casualidad que nosotras en febrero presentáramos una iniciativa y ustedes en noviembre

una estrategia contra la brecha salarial y puede ser también una casualidad que nosotras en marzo sacáramos una iniciativa y ahora antes de final de año

una estrategia para apoyar el sector de los cuidados todo puede ser una casualidad pero creo que lo que hay que hacer es un plan de choque medidas de verdad concretas

una serie de compromisos del gobierno hablaban ustedes de compromisos del gobierno que partían del acuerdo que ustedes firmaron en el año dos mil dieciséis

si esos compromisos estaban recogidos en ese acuerdo por qué

tardaron dos años en realizar esa estrategia por qué tuvo que venir elkarrekin podemos para impulsar

porque esta es la verdad y si no me lo explican en conclusión lamento de verdad y

el debate sobre las cuestiones que tenían que ver con los sectores feminizados donde estamos todas de acuerdo reconocemos el diagnóstico pero luego no hacemos nada

diciendo que hacemos tienen ustedes una oportunidad de apoyar medidas concretas un plan de choque para erradicar la precariedad para ayudar a todas esas mujeres que en sectores feminizados lo están pasando tan mal y creo que es un buen momento

eskerrik asko presidente anderea bueno no iba a salir pero por no reiterar

que la posición del grupo popular queda bastante clara con la primera intervención si cabe realizar alguna aclaración yo creo que es conveniente no dispersar y cuando podemos presenta esta iniciativa que tendrá

no vemos la necesidad de elaborar un plan de choque creo que además ya fue debatido recientemente este asunto y esgrimimos en ese momento

de fondo obviamente somos grupos con una posición política en asuntos concretos también muy diferenciada bestalde

legebiltzar honen eskumena hain zuzen ere creo que además en algunos aspectos concretos

muy críticos desde este grupo con el propio liderazgo de este gobierno con el desarrollo de la ley de servicios sociales

creo que también hemos dado varios tirones de oreja y recientemente

un acuerdo también en esta cámara en relación a la revisión del decreto de centros residenciales que además era un decreto con muchos defectos que además se había saltado claramente las previsiones de los contenidos de informes elaborados por el gobierno y señora molina y señora sánchez efectivamente también aquí hemos tenido conversaciones cruzadas quiero decir que de la misma forma que estaba hablando con ustedes estaba hablando

con otros grupos sí que es cierto que podía haber una coincidencia en que ustedes podían aceptar el cumplimiento de la moción a la que hacía referencia

en mi enmienda sobre los cuidados lo que

mención de la estrategia pero por otra parte sí que ustedes

que ahí coincidimos que no procede ese debate ya se produjo pero en cuanto a la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial

desde el primer momento y creo que la señora molina también hemos tenido conversaciones en este sentido no es un

que sepamos cómo va cómo se va avanzando no tenemos una evaluación es como si hablamos de que se siga desarrollando la ley de servicios sociales pues no cabe hablar de seguir desarrollando

de esta ley cuando prácticamente no se ha desarrollado creo que en ese sentido

finalmente hemos considerado más conveniente defender nuestra enmienda

señora sánchez o señora garrido cómo va a afectar a la brecha salarial el que más de

gipuzkoa vayan a afrontar su cuarto año de congelación salarial cómo va a afectar eso a ese intento de subir en el ranking y estar en el top five

y que además puede ser un reto compartido a mí me parece que eso es muy curioso y aquí se ha hablado de muchas cosas

y es que realmente eso es lo que está en el centro del debate que hoy elkarrekin podemos nos ha traído a este parlamento pero

una vez más en vez de afrontar esta realidad se opta por

otras estrategias comentar otros temas y salir del paso me parece muy curioso señora molina que usted que ha citado en más de una ocasión la estrategia

que nos ha dicho que es muy completa que además está dotada de recursos nos ha cifrado en sesenta las medidas que están contempladas me ha llamado la atención que no haya sido capaz

ninguna que afectara en concreto al colectivo de mujeres a las que se refiere esta iniciativa

con lo cual sí se necesita un cambio cultural

también son acciones y se necesita sobre todo coherencias entre lo que se dice y lo que se hace no sirve

porque feministas no es parecerse no se parece se tiene que ser hay que incorporar esa perspectiva y la economía feminista para traer los cuidados al centro de la política

señora garrido yo creo que la transacción entre el grupo nacionalista vasco socialista vasco el grupo popular en este caso hubiera sido muy sencilla

yo creo que al final no la ha firmado porque

no quería simplemente pero hubiera sido muy sencilla y hubiéramos podido

nosotros defenderemos nuestra enmienda a la totalidad señora kortajarena nosotros compartimos perspectiva

el grupo socialista desde luego si algo ha demostrado de su historia es que ha defendido la igualdad

estamos por luchar contra la brecha salarial efectivamente

medidas le he dicho tanto a nivel del gobierno de españa como a nivel del gobierno vasco

garcía desde luego no es algo que haya aparecido porque sí la elaboración de este

ya le he dicho en mi primera intervención que dentro del pacto de gobierno de la

grupo nacionalista vasco y el grupo socialista estaba ese compromiso para nosotros era importante el luchar contra la brecha salarial también he dicho en mi primera intervención que además con la aprobación de ese plan operativo

lo acordado en enero del dos mil dieciocho dentro de esta cámara pero es que existe ese plan operativo contra la brecha salarial existe

porque hoy es del sector de los cuidados mañana querrán que se haga el subplan de brecha salarial en el sector no sé qué a lo otro en otro sector tenemos un plan global contra la brecha salarial

todos los sectores afectados por esa brecha salarial donde sí estamos de acuerdo que también está el sector de los cuidados porque es un sector

no hace falta hacer un subplan para tratar la lucha contra la brecha salarial exclusivamente para el sector de los cuidados y dentro de no sé cuánto tiempo o dentro de quince días a ustedes se les ocurre que hagamos otro subplan para otra cosa no

contra la brecha salarial que recoja y que luche en todos los sectores donde efectivamente está afectada esa brecha salarial y eso es lo que existe ya y por tanto no se necesita ningún otro plan

diferente para conseguir ese objetivo y además le he indicado que también desde el gobierno de españa se están adoptando medidas con lo cual

la aprobación de ese subplan de choque y además ustedes lo que hacen es repetir cada cierto tiempo cuando no les sale una iniciativa

repetir cambiando algo cambiando un poquito lo que hicieron el siete de marzo era exactamente igual a lo que han planteado hoy solo que hoy hablan del plan de choque que en realidad es un subplan

es que nos parece mucho más coherente defender nuestra enmienda a la totalidad que va en la buena dirección y que además recoge que se apruebe a la mayor brevedad posible la estrategia vasca en el ámbito del sector de los cuidados ese es el camino y por tanto eso es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo sin empezar ahora a aprobar subplanes de choque que hoy es de una materia y mañana a saber

no tiene por objeto regular las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector y por lo tanto diciendo eso están engañando

luego también dicen que se cumpla la iniciativa de la revisión del decreto de residencias que se aprobó el pasado catorce de octubre cuando no ha pasado ni un mes por tanto aprobar una pnl que insta a aprobar otra pnl que fue aprobada hace tres semanas me parece un poco rebuscado pero bueno si no tienen nada más que aportar pues adelante luego también

pero claro parece ser que no les gusta y la tienen que meter en esta nueva enmienda ustedes también pasan de dar carnet de vascos y ahora

empiecen por reconocer que se hacen cosas y súmense a seguir haciendo más señora garcía

yo creo que le molesta eso que sea un gobierno efectivo que vela por los derechos de las personas y por cierto

dice la señora garcía en su iniciativa que es muy clara y muy concreta sí pero es que no es la solución asúmalo dice que hay que dar soluciones y por supuesto que hay que darlas pero viables y realistas no como el plan que ustedes proponen hoy y luego

y ya sabemos que también ustedes han venido aquí a darnos lecciones de la nueva política

no sé si estábamos hibernando o dónde isiltasuna mesedez pero a juzgar por los resultados electorales creo que la sociedad no opina lo mismo eskerrik asko molina

gracias señora presidenta señor lehendakari consejera señorías esta iniciativa viene dada a raíz de la decisión adoptada por la administración americana dirigida por el señor trump de imponer aranceles a los productos agroalimentarios españoles

la iniciativa americana la posición negociadora europea responde a una medida injusta y perjudicial para el sector agroalimentario español aranceles que afectan especialmente a productos como los vinos el aceite las aceitunas productos derivados del porcino los quesos productos españoles

valor económico en su conjunto hay que recordar que la lista de aranceles y la decisión de aplicarlos y se adopta como sanción por parte de estados unidos a aquellos países europeos que han ayudado o han concedido ayudas al fabricante airbus competidor de la estadounidense francia alemania reino unido y españa son los miembros del consorcio airbus y por tanto los más afectados por estas tasas

trescientos millónes de euros en vinos cuatrocientos millónes

según el ices son los más voluminosos

solo les afecta a los quesos y licores en italia quesos yogures y mermeladas en grecia

que como les digo no va a ser aplicada en grecia y en italia dado que los gobiernos de estos países negociaron de manera

y consiguieron dejar fuera de las tasas aquellos productos más afectados como por ejemplo el aceite de oliva muy importante para ambos españa se ha dormido

y esto ha provocado un profundo malestar a los sectores productores afectados

tanto las asociaciones respectivas los representantes de muchas comunidades autónomas se han quejado por esta aplicación de los aranceles a nuestros productos

hace meses que los sectores afectados eran conscientes de la situación que se podía generar tras el anuncio de la administración americana de aplicar dichos aranceles en el mes de octubre de este año que ya se han empezado

gravemente y así lo trasladaron al gobierno de españa y al ministro planas transmitieron al gobierno el conocimiento que tenían

de estos aranceles sobre todo de aquellos que más les perjudicaban pero nadie les hizo caso coincidían varios hechos el gobierno en funciones débil ante las negociaciones internacionales y además

impasible tarde nos hemos dormido decían los representantes sectoriales

anunciados por donald trump el gobierno de españa pidió amparo a la unión europea pero la unión europea se mostró pragmática en este asunto

tendrá que defender sus propios intereses lo que ya llevaban meses haciendo italia y grecia en este escenario españa parte con desventaja planas viajó a bruselas en busca de amparo y vino sin nada en las manos

anteriormente que cada país tenía que negociar individualmente

en el aceite en los vinos y productos porcinos se han librado en otros países por lo tanto

directos van a trabajar van a exportar en mejores condiciones que nosotros con lo cual nuestra situación es débil y muy mala grecia tampoco ha salido mal parada de estas negociaciones les decía a cambio de determinados autorizaciones en defensa instalaciones de gas o expansión de la base naval

estos aranceles también italia ha negociado en materia de defensa desde el sector agroalimentario español se exige a la unión europea que adopte medidas contundentes para

y manifiestan lo injusto que es sufrir las consecuencias de una guerra comercial aeronáutica

a españa en estos productos como italia como grecia o portugal no se verán afectados por los aranceles

no queremos una guerra comercial con estados unidos pero si la inician

con todas nuestras armas reconocerán que el tono es chulito

nuestras relaciones con estados unidos solo nos hemos limitado a convocar al embajador de estados unidos en madrid y transmitirle el rechazo frontal de españa a las medidas anunciadas también la señora celaá anunciaba que calificó de inaceptables las sanciones planteadas pero hemos sabido

se ha puesto las pilas más vale tarde que nunca después de ver lo que otros países como les decía han hecho y han librado una parte importante de los aranceles el gobierno de pedro sánchez lo fio todo a europa

mal y ahora este gobierno parece que se abre a negociar no quiere elevar el gasto militar pero posiblemente haya otros temas como puede ser dejar morir la tasa google que sí puede llegar a un acuerdo

el gobierno vasco puede entrar también a participar en esa negociación porque al margen de algunas medidas que se han anunciado lo mejor que nos puede pasar es que

eso es lo mejor que nos puede pasar y por lo tanto tanto el gobierno vasco defendiendo los intereses de nuestros productos de nuestros vinos de rioja de los txakolis de los

debe de trabajar codo a codo con el gobierno de españa para conseguir que nuestros productos

unidos caerían un doce por ciento desde el grupo popular hemos presentado esta iniciativa que

se apliquen y que se negocie igual que lo han hecho otros países también instamos al gobierno vasco a que allí donde tenga oportunidad de participar

la aplicación de estos aranceles para nuestros productos especialmente para nuestro vino de rioja alavesa

también instamos al gobierno vasco que junto con el resto de administraciones competentes busquen alternativas de exportación a otros países así como la promoción a nivel local regional y nacional esta

creemos que tenemos una oportunidad y que no la debemos dejar pasar y que también nuestro gobierno se tiene que poner codo a codo con el gobierno de españa para defender ante estados unidos la defensa de nuestros productos de los aranceles por lo tanto

de todas es que no se apliquen los aranceles después habrá que ver cómo diversificamos la exportación pero

sailburu legebiltzarkideok guztioi egun on hoy debatimos una proposición no de ley del grupo popular contra

por trump a españa y por lo tanto a euskadi cómo oponernos a una propuesta de este tipo y cómo crear debate de una cuestión que no genera debate sino consenso

en nuestra opinión se podría haber tramitado perfectamente como una declaración institucional y hubiera sido suficiente cómo estar

el gobierno de españa actué junto con la unión europea para evitar estos aranceles cómo estar en contra de que nuestro gobierno vasco proteste en los foros correspondientes

otros países para la exportación o cómo estar en contra de promocionar el consumo interno de estos productos para evitar su dependencia de los vaivenes del comercio internacional nadie está en contra de esta cuestión nadie puede estarlo aurre egin behar diegu bai neurri

interes ekonomiko nagusien alde el debate de hoy como digo no es sobre la proposición no de ley presentada por el grupo popular que no tienen ningún debate el debate es de dónde nos vienen estos aranceles de dónde nos vienen estos aranceles

no de ley arbitrarios que diría nuestro grupo se dice que el señor trump es proteccionista pero no es proteccionista

no es proteccionista para exportar para exportar el señor trump es un liberal convencido no es un problema esto del señor trump y yo diría que no es un problema tampoco de estado unidos

arbitrarios e injustos el problema hoy el debate que no está y que no creo que vaya a lanzarse aquí por parte de los grupos que vamos a apoyar esto

es el del papel de la organización mundial del comercio a día de hoy en este mundo en el que vivimos

la organización mundial del comercio autoriza a que estados unidos

de euros es la organización internacional del comercio la que ha permitido esta injusticia contra nuestros productos vascos

es las reglas del comercio internacional a día de hoy las reglas que bendicen el partido popular

todos y cada uno de los días en la eurocámara y en el congreso de los diputados y en todos aquellos sitios donde tienen oportunidad

la organización mundial del comercio no es un comercio justo no es un comercio para el mutuo enriquecimiento

y agrícolas que se oponen a esa dominación y estos aranceles que nos vienen hoy vienen de ayudas ilegales dadas por nuestros países europeos al airbus y por lo tanto unos aranceles que está permitiendo la organización mundial del comercio y que hacen que estados unidos gracias a la organización mundial del comercio en lugar de sancionar

a quien esté sancionando es al sector primario vasco porque de alguna manera en euskadi lo que podemos decir es que tenemos

que va como un tiro gracias a las ayudas ilegales y que quien va a pagar ese buen estado

es el sector primario vasco es esto justo no pero se tiene que decir porque si no la gente no se está enterando de nada de lo que está pasando aquí lo que está pasando aquí es que hay una injusticia flagrante para con nuestro vino nuestro txakoli y nuestro quesos

vamos a votar a favor pero de dónde viene esta injusticia si hablamos solamente de las consecuencias y no hablamos de las causas nos estamos quedando con la mitad de la historia

nada de lo que está pasando hoy en día en el mundo con el comercio internacional con las reglas de la organización internacional del comercio los aranceles no son un problema los aranceles son simplemente una herramienta que permite compensar desequilibrios cuando se hace comercio entre mercados desiguales

permiten compensar los problemas los efectos negativos o perversos sobre las comunidades locales el problema no son los aranceles son los aranceles injustos y arbitrarios

como estos o el otro problema es que los aranceles no existan que esos son los acuerdos de libre mercado que no haya aranceles entonces cuando aquí se habla de que los aranceles son malos se está introduciendo

subliminal que es siempre el mismo

el mismo es el de defender las normas del comercio internacional injusto gure ustez muga zergak

diskurtso sakon bat guztiz azaltzeko hemen gertatzen ari dena nuestra posición repito va a ser la de apoyar

lamentamos que no hayamos podido llegar a una transacción quizás más amplia que pudiera recoger todas las cuestiones que quedan pendientes aquí que son las de que no tenemos un problema solamente con los aranceles que nos pone el señor trump tenemos un problema con el comercio internacional

desde luego la solución será solamente parcial y no estaremos entendiendo la complejidad total de la cuestión que estamos abordando
ahora mismo en este debate eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

bai eskerrik asko tejería andrea para mis riñones esto de bajar las escaleras rodando no es muy bueno

desde luego es un poco pretencioso intentar desde esta cámara cambiar los acuerdos y las normas de comercio internacionales ojalá se pudiera yo desde luego creo que es un buen momento para seguir debatiendo de hecho hace pocos días

hablábamos de este mismo tema en las juntas generales de álava traíamos los aranceles a las juntas generales de álava yo quisiera hoy decir a la señora lópez de ocariz que lo primero igual tendríamos que enfocar un poco más la cámara como acercarla un poco más porque hablamos de trump de estados unidos de ese mercado

yo hoy me voy a centrar un poco más en el mercado local porque viendo la foto que tenemos en el mundo la verdad es que a mí

sino me tiemblan las piernas porque veo a trump y a los estados unidos haciendo una guerra fría comercial y unos acuerdos comerciales

desde luego nos venden incertidumbre nos venden estabilidad cero nos venden una pelea por materias primas que efectivamente la brecha cada vez está más grande entre los

que sí que producen las materias primas pero que no se quedan con los beneficios y quienes no producen las materias primas y sí efectivamente se quedan con los beneficios

y desde luego podríamos decir también que el hambre cada vez es mayor

para esa gente que produce ese es el primer sector que tenemos en el mundo

pues hace unos años nos vendían la liberalización de los mercados como la panacea nos vendían la liberalización de las cuotas como la panacea

en unos momentos de sujetar por decir el mercado y de protegerlo

en eso el sector primario vasco no jugaba en igualdad de condiciones ha salido perdiendo está indefenso y yo creo que hasta ahí la foto un sector primario que cada vez va a peor

culpa de trump ni de estados unidos sino de la falta de valentía y la falta de acción de diferentes gobiernos decía usted que españa se ha dormido

españa lleva dormida muchísimos años y de hecho su sector primario no hay más que verlo cómo va hacia atrás y cómo está

de las zonas rurales cuando hablamos del tema de los aranceles de estados unidos hay que decir que es verdad que han puesto un veinticinco por ciento a la producción digo el vino pero tampoco hay que olvidar el txakoli que es importante

entendemos que a perro flaco todos son pulgas o sea lo que faltaba el vino y el sector del vino ya están viendo cómo manejar o cómo

no hay arancel entonces el daño va a ser relativo al sector vitivinícola pero bueno el txakoli sí que va a necesitar apoyo y rápido

un mercado común para todos va a haber unión vamos a pelear no ha sido para nada eso ha sido un fraude y yo diría que mucho peor es que trump negocia como un gran empresario mientas la unión europa de manera tecnócrata se podría decir pero desde luego no hace frente a todo esto

tan sencillo como eso entonces más inestabilidad más incertidumbre y qué es lo que tenemos aquí

hace un momento el señor tellería decía en este mismo

alimentaria o algo así no es tan sencillo como intentar

se bebe el setenta y dos por ciento de su vino aquí nos bebemos el doce por ciento

pero que tenemos mucho que hacer y que la brecha es muy larga y muy alta y efectivamente

efectivamente encima de la mesa eso es así así que como grandísimo potencial de crecimiento de momento lo tenemos aquí dentro también hacia fuera cómo no tenemos

estados unidos tenemos un montón de países y tenemos otro problema que el vino y el txakoli en este caso son productos muy sensibles al precio eso es así

no pueden competir y menos cuando tenemos una denominación de origen una marca rioja que cada vez está

esta mañana intentaba comprar yo un vino por internet que no suelo hacer no sé ni cómo se busca casi pero lo he intentado y entonces me he puesto a buscar y he encontrado un crianza

quiero decir que mientras estos vinos valgan este precio pues difícilmente vamos a poder mandar a estados unidos y que la gente los tenga como calidad por qué porque en rioja ahora mismo la calidad bueno vamos a ponerlo un poco en duda se está apostando por la cantidad

por diferenciar y por esa a veces muy bien llamada excelencia

desde luego que hay que actuar de manera global pero aquí habrá que pedirle cuentas al

y desde luego al gobierno vasco pero le voy a decir una cosa creo que

hoy llegamos aquí y para nada

no solamente que es poco ambiciosa sino que creo que está incluso rebajada bueno creo que está no está rebajada porque además me la he traído porque la pensaba leer desde luego no voy a entrar a leerla

me da hasta un poco de pena me da hasta un poco de pena porque que en álava en las juntas generales se sea más ambicioso que en esta casa que realmente es donde se tienen cosas que hacer pues me da un poco de pena pero bueno voy a valorar un poco lo que ya se ha hecho porque efectivamente la oposición

podemos decir las cosas cuando se hacen bien y en este caso creo que aprobar la moción de hoy al gobierno le es cómodo porque de hecho lo que se plantea ya se ha hecho es sencillo también cuando se hacen mal las cosas se dicen y ya está somos oposición para eso estamos y la tercera que siempre hay un tres

visibilizar al sector siempre es necesario de hecho es prioritario

cuando hablamos de diversificar mercados efectivamente tenemos estados unidos un mercado que hoy por hoy no es la panacea es

después de suiza y creo que de alemania no del reino unido reino unido suiza

puede ser muy jugoso pero de momento hoy no se están jugando las alubias en el mercado de estados unidos efectivamente decía que su moción hoy queda un poco corta

los aranceles no está evitarlos en manos del gobierno de españa ojalá estuviera pero creo que no está el segundo

que lo hacen no tengo ninguna duda en la tercera el parlamento insta al gobierno vasco a que acuerde con las distintas administraciones todas las posibles acciones para la exportación a otros países así como la promoción del consumo interno

creo que ese punto lo compartimos absolutamente insistimos

vamos a dejar el externo de momento en la medida que se pueda y el último el parlamento vasco remitirá a este acuerdo a la unión europea al gobierno vasco y diputaciones y sectores me parece un poco poco

en álava desde luego que no tiene nada que ver con esta se habla de preocupación

se hablaba de defender la máxima implicación de los intereses económicos y comerciales de todos los productos

incentivar el consumo interno me da pena porque hoy nos quedamos

porque efectivamente siempre que hablamos del sector productor cualquier medida aunque esté caducada siempre es buena entonces todavía sigo teniendo dudas espero a ver si hay turno de réplica y si no pues no sé lo voy a consultar

presidenta señorías la iniciativa que hoy nos ocupa tiene un responsable un responsable único se llama donald trump y es la política de la desestabilización en muchos segmentos

de la vida internacional en este caso de las relaciones comerciales y por lo tanto aunque aquí hemos oído muchas cosas

opiniones diferenciadas a la hora de enfocar este asunto espero que todos compartamos que la responsabilidad de una medida dañina como la que ha planteado donald trump es responsabilidad de él y

la medida en que nos afecta y nos afecta mucho porque actúa de una forma importante sobre nuestra actividad comercial es

tenga un pronunciamiento un pronunciamiento que más allá de la hojarasca por lo que he escuchado en las distintas intervenciones hay muchos puntos de coincidencia puede haber quien

más allá puede quien considere que el procedimiento pudiera haber sido otro no necesariamente una una declaración institucional pero bueno más allá de la forma o de pretensiones que hoy no están escritas lo que se plantea a esta cámara es que nos pronunciemos sobre la proposición no de ley del partido popular que refleja bien

que es lo que se está haciendo ciertamente el gobierno de españa desde que surgió este problema

miembros del gobierno en funciones esperemos que en poco gobierno ya de pleno derecho y además gobierno progresista bueno pues se puso

esta avalancha que se nos venía muy específicamente hacia el sector del vino y hacia el sector del txakoli estados unidos

y representa para el sector de rioja también el tercer mercado

por lo tanto es muy importante ese mercado para los intereses vascos del sector vitivinícola

razonable que digamos que hay que enfrentarse a esos aranceles que hay que buscar también

rehén de mercados únicos o de mercados mayoritarios

hay muchas contradicciones en el comercio internacional y por lo tanto hay que estar permanentemente buscando la diversificación de los mercados igual que la diversificación de los productos

y mejor en el conjunto del mundo para una sociedad que económicamente es tan exportadora como la nuestra se plantea una colaboración interinstitucional entre las distintas administraciones lo cual es también razonable porque es un problema que nos afecta por igual a todos con independencia de nuestra forma de

institucionalmente y por lo tanto vale

se haya planteado cierta dosis de desahogo o de crítica pero más allá de esos elementos que son como he dicho un poco

razones para unánimemente sacar adelante esta posición política y yo espero que así se haga y por tanto como se ha podido

ninguna enmienda al respecto nos parecía bien el planteamiento dispositivo inicial que se hizo por parte del partido popular y es lo que vamos a apoyar muchas gracias

egun on berriro a pesar del golpe que ya está suponiendo la decisión del gobierno

pero la decisión ha sido exclusivamente del gobierno de estados unidos

esta proposición no de ley no me resulta compleja pues por una vez

sino que en el fondo se alaba la prontitud de su actuación ante un problema muy serio lo que es incuestionable y por eso entendemos que debe ser apoyado

expresó su preocupación y valoró el impacto económico de la medida en el sector alimentario en siete coma seis millónes de euros y el día diez

la consejera de desarrollo económico con su equipo se reunía con los representantes de los sectores alimentarios afectados y la primera

para la excelencia vitivinícola que se ha venido a denominar

hasta fin de año para reforzar las estrategias de las bodegas de rioja alavesa y de las tres denominaciones de txakoli las que están llevando a cabo en el mercado estatal e internacional

los mercados potenciar las visiones inversas y reforzar las ayudas públicas es decir un paquete de medidas en el mismo momento en que surge el problema todo eso en muy pocos días me aceptarán que aunque el gobierno siempre lo hace esta vez es tan evidente que aunque les cueste tienen que reconocer que se ha actuado con celeridad y eficacia por todo ello

de reclamar al gobierno español y a la unión europea que se apliquen en una materia que les compete no deja de sorprender que en la propia unión europea y esto a mí de verdad esto sí me ha llamado la atención haya países que son penalizados por aranceles y otros no

por la actuación arbitraria de un país tercero en este caso estados unidos cuyas medidas van a suponer un foco de tensión interno en la unión europea que no parece que nadie de momento quiera atajar esta competencia interna injusta puede llevar a desajustes que debe ser la propia unión europea

métodos de chantaje para romper la unidad de la ue por eso

cuanto antes un asunto que en caso de durar puede provocar un conflicto de difícil resolución dentro de europa y que lo que es peor utiliza a los productores

ningún viticultor de rioja alavesa ni ningún txakolinero vasco son responsables de los trueques arancelarios y de otro tipo que se vienen gestionando torticeramente por el mundo debido a actuaciones irresponsables

pero son ellos los que están sufriendo las conclusiones de esas acciones injustificadas dicho esto y aunque es cierto que en caso de que se cronifique la situación habrá que trabajar para buscar nuevos mercados de exportación ampliar los actuales y profundizar en el mercado interior

de propuestas que sin criticar al gobierno vasco que no pueden hacerlo porque no encuentran motivos sugieren modificar la política de internacionalización

en el caso de la internacionalización el gobierno viene desde hace muchos años apoyando la política de diversificación de mercados con el objeto entre otras cosas de minimizar los riesgos pero al tiempo deja lógicamente que sean los operadores los que decidan a qué mercados dirigirse lo cual es lógico porque en caso contrario

estaríamos coartando a las bodegas su capacidad de libertad de elegir el país

de estados unidos no es una causa es una causa sobrevenida que no es culpa de los operadores ni del gobierno vasco aunque alguno así lo pueda pensar

cansino porque ustedes tienen la documentación de la multitud de campañas que anualmente organiza el gobierno y las diputaciones de consumo interno y fracasan

el consumidor el consumidor hay territorios que elige otros vinos y no estos

porque no se ha incrementado suficientemente y siempre nos olvidamos de los ciudadanos siempre echamos la culpa a las instituciones a las organizaciones gubernamentales y no pensamos que los ciudadanos las ciudadanas somos libres para elegir e ir al país que queremos consumir la carne que queremos y beber el vino que más nos apetece dicho esto no me queda más que resumir

injusta y arbitraria que pone a nuestros productores de vino en una posición delicada en tanto su mercado norteamericano es relativamente importante para muchas bodegas

debe de intentar atajar el problema cuanto antes y la propia unión europea debe actuar con prontitud y decisión en tanto se ha generado una asimetría

y que puede provocar un conflicto a medio plazo de superior magnitud entre tanto conclusión el gobierno

seguirá actuando con celeridad con eficacia ante las consecuencias

las consecuencias de una decisión de un país

que sabemos que nuestro grupo desde luego y que el sector afectado agradece mucho su trabajo muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

sí gracias señora presidenta si me lo permite desde el escaño

de la mía en muy poquito hay alguna palabra que no pero es vamos las comas y poco más por lo tanto

de lo que se trata aquí no es de abrir un debate del comercio en general internacional que ese será un debate muy interesante pero en otro momento estamos primero que tenemos un problema que

que hay maneras y modos de evitar los aranceles como lo han hecho otros países y creo que la presión que ha hecho todo el sector a nivel de españa con el gobierno de españa

de alguna manera ha impulsado

con estados unidos por lo tanto eso es bueno y también es bueno que se sume a esa negociación las comunidades autónomas y es por lo que instamos a que nuestra comunidad autónoma

lo que sea oportuno para defender nuestros productos y que también podamos evitar los aranceles

que creemos que al margen de otras medidas que se puedan poner a posteriori esa sería la mejor manera de

bueno yo les animaría a que voten a favor porque creo que hemos puesto hemos expuesto un problema del sector primario en esta cámara creemos que hay vías de solución y es lo que hemos hecho

vistas las enmiendas son muy parecidas y son tres puntos también la suya y pedimos lo mismo

agradecer nuevamente a los grupos que apoyan la iniciativa nada más eskerrik asko

nada solo uso dos minutos y esta vez no me he caído o sea que ni tan mal he llegado al atril sana y salva lo primero

sin echar muchas flores más porque tampoco ha sido para más sin más porque la situación de rioja alavesa desde luego no me negarán que no está boyante simplemente un dato en el año mil novecientos noventa y uno noventa y cinco había setecientos bodegas familiares hoy quedan doscientos yo creo que eso es bajar creo

somos libres hasta que llegan los aranceles y tenemos que pagarlo

estoy un poco dolida porque no he tenido la oportunidad no por nada sino porque en juntas generales de álava hubo un acuerdo entre podemos partido popular y euskal herria bildu que lo tengo aquí

y hoy llego aquí y no solamente me encuentro con que usted ha negociado con el gobierno sino que no hemos tenido oportunidad ni siquiera de meter

entonces me da un poco de pena ya lo he pensado sí claro que vamos a apoyar porque efectivamente no dice nada ni nos condiciona a nada pero desde luego yo sí que agradecería un poco más de empatía política más que partidismo al uso y nada más porque nosotros siempre estamos dispuestos nosotras siempre estamos dispuestas a echar una mano a participar y desde luego si tenemos que dejar pelos en la gatera lo dejamos sin ningún complejo

aclarar primero hombre si no me dejan hoy echar flores al gobierno

está de acuerdo en que lo han hecho bien y qué es lo que han hecho bien ante un acontecimiento se provocan unas consecuencias y esas consecuencias las está intentando atajar y hoy venimos a hablar de eso insisto en que las causas más grandes o menos grandes la omc

por cierto acuerdo con el que había una persona y dos organizaciones en contra

podemos y trump eran los tres que estaban en contra de aquel acuerdo que a lo mejor hoy llevado a otra situación distinta de estos aranceles y sin más

y que vamos a apoyar la propuesta porque creemos que es razonable efectivamente

son muy similares pero las juntas generales y el parlamento vasco señora lópez de arroyabe toman sus decisiones cada uno en su contexto no es como usted ha dicho que

generales que en esta casa que es donde hay cosas que hacer hay cosas que hacer en las dos usted ha dicho textualmente esa frase y mire le voy a decir solo una cosa a lo largo de este debate lo he estado contando en su grupo en sus escaños

creo que usted tiene dentro de su grupo que preocuparse más para hacerles trasladarles el interés del sector agrario no hablo de los demás

del hogar parece ser isiltasuna mesedez

no es directamente proporcional las horas extras no son tenidas en cuenta como tampoco

al igual que las empleadas dedicadas al trabajo del cuidado deberían pero no lo tienen en muchas ocasiones sigue siendo la empleada quien asume la totalidad del coste incluso cuando la obligación es

todavía tenemos testimonios de mujeres que aseguran que se sienten obligadas

la parte contratante establezca las horas el salario las tareas a realizar el tipo de jornada aunque tras la firma se apalabren unas condiciones

más exigentes o menos ventajosas que las estipuladas en el contrato escrito muchas no tienen una confirmación por escrito de las condiciones laborales

la totalidad de las internas ya que para ellas la disposición de un contrato escrito es fundamental de cara a la regulación de su situación y

según los datos de ath en dos mil dieciocho un cuarenta y dos por ciento de quienes trabajan hasta cinco horas semanales no estaba de alta en la seguridad social

lo que viene favorecido por la desproporción entre el salario recibido y la cuota a pagar

empeora porque la cuota mínima se ha incrementado en un veinticinco por ciento a la hora de la cotización surgen varias cuestiones y la principal es el desconocimiento del sistema de seguridad social y la escasa conciencia de la obligación de cotizar y a la hora de hacerlo de cómo hacerlo

que el problema está en la base en la concepción misma del empleo doméstico cito textualmente cabe plantear la posibilidad de comenzar a ser más exigentes con el sector en general y apostar por minimizar los desajustes actuales

de toda la economía y también el único que no genera prestación por desempleo el sistema de cuidados

indefinidamente para el sostenimiento con un colectivo de trabajadoras a las que deliberadamente y mediante una legislación discriminatoria se mantiene en condiciones de pobreza vulnerabilidad e infra protección

como les decía hace tiempo que las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar están sobre la mesa

han venido muchas veces las trabajadoras para comparecer y hoy las tenemos tanto aquí dentro como manifestándose por sus condiciones laborales hace un rato ahí fuera y lo hacen por sus condiciones laborales y porque se cumpla la ley así que mis primeras palabras son para saludarlas y para agradecer el trabajo que hacen porque es un empleo imprescindible para la vida y porque se les valora poco o nada y justificación de eso es precisamente la iniciativa que hoy ha traído el grupo eh bildu a debate porque la señora etxebarrieta nos pone sobre la mesa

de hogar y no podemos hacer otra cosa que no sea apoyarla

no es muy normal que permitamos que sigan existiendo trabajadoras de primera y trabajadoras de segunda

en su inmensa mayoría mujeres cuyas condiciones de trabajo además de ser precarias tienen mucha menos protección que en el resto de trabajadores a pesar de algunas conquistas obtenidas en la última década de años de reivindicaciones y de lucha de las trabajadoras del sector en los planteamientos que hemos defendido siempre desde elkarrekin podemos está

de las mujeres que desempeñan esta labor en el ámbito del hogar es una prioridad para nosotras en primer lugar porque entendemos que es indispensable el reparto de los cuidados y de los empleos y en segundo lugar porque sencillamente se trata de trabajadoras asalariadas contratadas y como tal

los mismos derechos que el resto de trabajadoras independientemente de que su trabajo sea generador o no de plusvalía independientemente en definitiva de que estos trabajos pertenezcan al ámbito de los cuidados independientemente de que no lo hagan con la parte productiva

trabajadoras y trabajan por lo tanto tienen que tener los mismos derechos entendemos además que las trabajadoras que la premisa fundamental en el empleo de las personas trabajadoras del hogar debe de ser

con la misma protección que el resto de trabajadoras en este sentido nuestro grupo ya trabaja en el congreso de los diputados al igual que

en esta cámara entendemos asimismo que hay una importante invisibilización y una desvalorización del trabajo doméstico y del trabajo de los cuidados como ya hemos tenido la oportunidad de debatir hace un rato responde a un modelo socio laboral que no se ajusta al que nosotras defendemos

biológico sino el resultado de la construcción social de las diferencias de género que convierte a las mujeres en sujetos femeninos orientados fundamentalmente hacia el trabajo de la reproducción y a los hombres

en el trabajo de la producción tal proceso de socialización encorseta en estereotipos diferenciados y posibilidades de vida ambos géneros posicionando a las mujeres

ya que en esa socialización diferencial de género se consigue que esas diferencias se conviertan en desigualdades y que además estas

el trabajo reproductivo merece ser valorado y cuantificado el trabajo de los cuidados debe ser asumido por el conjunto de la sociedad y no solo en exclusiva por la mayoría de las mujeres y podríamos hablar de otros muchos debates que son conocidos de sobra en esta cámara sobre los regímenes especiales de cotización

porque para empezar cotizan por debajo de lo que cobran pero no quiero detenerme en los detalles técnicos porque entiendo que no es lo que procede en este debate y porque la señora etxebarrieta ya ha explicado de forma muy adecuada

sabemos también que se ha debatido en numerosas ocasiones y que hay entre todos los partidos que estamos aquí al menos en el discurso como pasaba en el anterior punto al menos en el discurso

a negar que es indispensable que se modifiquen las leyes que cronifican esta serie de injusticias pero sí quiero detenerme en las consecuencias de que estos pasos

a pesar de que lleguemos a acuerdos no se tomen las medidas pertinentes y quiero detenerme porque las trabajadoras del hogar que se desloman limpiando escaleras cuidando de nuestros hijos e hijas

lo están pasando mal porque es un trabajo penoso porque se juegan la salud y qué tienen a cambio

incierto qué encuentran de la noche con qué situación se encuentran de la noche a la mañana

son despedidas no tienen derecho a paro y encima lanbide les recorta

siempre prevalece sobre sus voces y por no poder muchas no tienen acceso a la inspección de trabajo para denunciar vulneraciones de derechos y eso es un problema un problema que un cien por ciento no podemos resolver

pero es un problema que tenemos la obligación de abordar

es por ello que queremos y creemos que es obligatorio defender la integración del régimen ordinario de la seguridad social no tiene ningún sentido seguir como estamos

de este grupo pero créanme que no tienen cabida nosotras queremos

porque esto se lleve adelante sin demora el abordaje de los cuidados es indispensable como un reto de país como un reto de país como una responsabilidad colectiva porque hay que sacar esto del ámbito privado de una vez y nuestra aportación a este debate por completar lo propuesto por la representante de eh bildu es la exigencia del cumplimiento del acuerdo al que se llegó en este parlamento en junio del año dos mil dieciocho y para el cual nos parece que vamos tarde y mal ya son casi es casi año y medio y sí que está en nuestra mano el cumplir los acuerdos de los que nosotras mismas como parlamento nos dotamos y en esto sí me quiero detener y me quiero detener porque es su responsabilidad señora san josé señoras y señores del gobierno o de los que quedan escuchándome y no se está haciendo lo suficiente y ya no se puede esperar más ustedes tenían varias obligaciones y todas

está incumplido y va con mucho retraso aunque parece que va a venir la entrega del diagnóstico de la situación de las trabajadoras de hogar y que tenía que haber estado aquí hace ya casi

y no avanzamos pero además de ese hay otros incumplimientos que ni siquiera aparecen entre las que ustedes contemplan como obligaciones y eso a todas luces no

las mujeres trabajadoras de hogar son personas trabajadoras y merecen toda nuestra protección y merecen tener intactos sus derechos laborales no como si fueran trabajadoras de segunda ni de tercera no como si fueran menos válidas o por supuestos menos importantes es por ello que entendemos que es sensata la propuesta que hoy nos ha traído la señora etxebarrieta que hacen además

apoyaremos independientemente de eso la enmienda que hoy nos han traído los grupos que apoyan al gobierno estamos de acuerdo

para variar insuficiente no es suficiente hay que seguir trabajando y entendemos que la propuesta que hoy nos presenta eh bildu es un buen camino

en el pleno hemos debatido en numerosas ocasiones sobre condiciones de trabajo de las empleadas de hogar en concreto lo debatimos en los plenos de dos de febrero y treinta mayo del dos mil diecisiete y también el siete de junio

que realicé en febrero del dos mil diecisiete hacía referencia a cómo había cambiado la legislación referente a las empleadas de hogar a lo largo de estos años siendo la primera normativa del año mil novecientos ochenta y cinco

en el año dos mil once y que inició los pasos para la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar con los trabajadores del régimen general de una forma gradual y hablamos de la importancia de ratificar el convenio ciento ochenta y nueve de la oit de dieciséis de junio del dos mil once

en los mismos se reconoce el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo y garantiza que los trabajadores y trabajadoras del hogar sean tratados en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores de cada país

del grupo nacionalista vasco socialistas vascos eh bildu y elkarrekin podemos

para que procediera la ratificación de ambas para su posterior transposición a la normativa estatal el partido

pero se aprobó con el apoyo del resto de grupos políticos de la cámara y seguimos creyendo en la necesidad de llevar a cabo esa ratificación y eso a pesar de que muchas de las cuestiones recogidas

del dos mil once están recogidas dentro de este convenio ciento ochenta y nueve es por ello por lo que el programa del psoe de las elecciones generales

con el objeto de consolidar la igualdad de derechos laborales y de seguridad social de las personas en su inmensa mayoría mujeres que trabajan como empleadas domésticas por otra parte y dado que el último estudio referente a las condiciones de empleadas de hogar de había realizado en el año dos mil once se consideraba importante

ese informe diagnóstico de la situación de las trabajadoras de hogar en la comunidad autónoma vasca incluyendo trabajadoras y empleadores y de las necesidades a las que dan

quiero señalar que el acuerdo del siete de junio del dos mil dieciocho

desarrollando osalan ha entregado los estudios que se requerían al departamento de empleo y el departamento de empleo y políticas sociales ha hecho los cambios correspondientes es por ello que consideramos que no hay que exigir su cumplimento de manera urgente porque ya está elaborado se he elaborado también la guía de prevención de riesgos de trabajo

desde osalan pero no han sido las únicas actuaciones el departamento de trabajo y justicia en esta legislatura han efectuado diferentes actuaciones se han llevado a cabo campañas desde el gobierno vasco de información tanto a personas empleadas como empleadoras

guía básica de prevención de riesgos laborales para las personas trabajadoras del hogar elaborada por osalan

doméstico organizado por el departamento de trabajo y justicia los días tres y cuatro de octubre de este año en bilbao

así como del control sobre actividades de agencias de empleo del

que se presenten por cualquier trabajadora afectada en la iniciativa del grupo eh bildu solicita en su primer punto que el parlamento inste al gobierno de españa a establecer de inmediato mecanismos para la cotización legal en función del salario mínimo

como lo que corresponde retroactivamente a años anteriores y nosotros no lo consideramos necesario

a continuación el salario mínimo interprofesional como su propio nombre indica marca la retribución mínima bruta legal que recibirán todos los profesionales incluidas las empleadas de hogar por la actividad desempeñada su valor toma como referencia la jornada completa

de un real decreto a través del real decreto

publicado el veintiuno de diciembre del año pasado el gobierno fijo

es de novecientos euros mensuales brutos distribuidos en catorce pagas con un incremento del veintidós coma tres por ciento del año anterior

e decir en el dos mil dieciocho era de setecientos treinta y cinco

donde se ha producido un mayor incremento de ese salario además en el caso de las empleadas de hogar que trabajen con régimen externo

los siete coma cuatro euros brutos por hora efectiva de trabajo y se deben de incluir la parte proporcional de festivos y de pagas extras es decir que en la actualidad desde enero del dos mil diecinueve se garantiza como mínimo el pago del salario mínimo del cómputo anual por debajo del cual no es posible descuento alguno por salario en especie

no vemos ningún sentido la propuesta que se realizaba por otra parte además no vemos el que se tenga que realizar efectos retroactivos en las cotizaciones es que además ustedes están pidiendo algo que va en contra de lo que establece la normativa vigente porque los empleadores no pueden fuera del periodo voluntario de pago pagar ningún tipo de cotizaciones con efectos retroactivos porque la normativa

solamente se podría efectuar abonos retroactivos a través de actas de liquidación elaboradas por la inspección de trabajo con lo cual lo que

pidiendo no tienen ningún sentido el punto segundo de la enmienda transaccional el parlamento vasco insta al gobierno vasco de españa a establecer una nueva regulación laboral que no discrimine a empleadas y empleados que integran el sector del hogar y el ámbito de cuidados no estamos hablando aquí de dos normativas diferentes por un lado está el sistema especial

de empleadas de hogar que está vigente dentro del régimen general de la seguridad social desde el uno de enero de dos mil diecinueve está la normativa del sector de los cuidados la normativa del sector de los cuidados se aprobó una normativa específica en el año dos mil once casi a la vez que se aprobaba la de la normativa de empleados de hogar

el partido popular la dejó en suspenso durante años pero se ha vuelto a recuperar en enero

esas cotizaciones para los cuidadores por parte del gobierno de pedro sánchez dentro del punto tres se insta al gobierno vasco

y trabajadores y reforzar la labor permanente de la inspección de trabajo

anteriormente eso ya se está realizando en estos momentos con lo cual tampoco vemos ninguna necesidad de ello y en el punto cuarto de la enmienda transaccional

dicho a lo largo de mi intervención que también se está cumpliendo es por ello por lo que vamos

donde el parlamento vasco insta al gobierno de españa a ratificar el convenio ciento ochenta y nueve sobre trabajadoras y trabajadores domésticos del dos mil once y también a continuar informando a las personas trabajadoras de los derechos de cotización y a las personas empleadoras de sus obligaciones

justizia sozialaren garaia zabaltzen zen el convenio ciento ochenta y nueve y su recomendación doscientos uno son una materia de justicia social y dignidad constituye un sólido reconocimiento del valor social y económico que tiene el trabajo doméstico

de la que son objeto las y los trabajadores del hogar en los ámbitos de protección social y laboral el trabajo doméstico y de los cuidados

por su contribución de manera decisiva a la sostenibilidad humana de la vida a pesar de esta importancia supone una de las formas de empleo más invisibles

hoy nueve años después de que la oit adoptara el convenio número ciento ochenta y nueve

el gobierno de españa sigue sin ratificarlo el grupo eaj pnv en el congreso de los diputados ha defendido siempre las iniciativas en favor de esta ratificación

dirigida a reconocer y extender los derechos y protecciones fundamentales a millónes de personas que trabajan en hogares privados alrededor del mundo uste dugu

señora garcía comparto su reflexión yo creo que no hay ningún grupo que no quiera mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del hogar desde luego pero

gracias señora presidenta buenas tardes a todos

como se ha dicho ya aquí con relación a las

las iniciativas que se han debatido en esta cámara y muchas de ellas

en otras ocasiones además este colectivo su volumen real no lo conocemos ya que

se encuentran fuera de las cotizaciones de la seguridad social así por ejemplo en el año dos mil catorce la inspección de trabajo y seguridad social detectó algún caso de empleo irregular en una de cada

de hogares que tenían empleadas domésticas estamos

ante un sector que es cuantitativamente importante aunque a veces su entidad real no tenga reflejo en los datos de afiliaciones de la seguridad social porque como décimos en muchas ocasiones esos datos de afiliación no se conocen en toda su integridad algunos de los datos que voy a dar los he recogido del diagnóstico de la situación de las empleadas de hogar que ha sido realizado por el gobierno vasco y por osalan en mayo del año dos mil diecinueve y así se señala que en nuestra comunidad

como empleadas de hogar en el año dos mil diecisiete y

a través de esos datos que es un sector absolutamente feminizado

el cuarenta por ciento son personas extranjeras estamos

especial por las condiciones particulares en las que se realiza

de las personas que trabajan en el hogar por un lado es un ámbito o como décimos en el ámbito en el que desarrolla esa actividad el hogar familiar y también por otro lado

la relación tiene que haber entre empleador y trabajador ello es lo que justifica en algunas ocasiones esa regulación específica y diferenciada tal y como decía el decreto mil seiscientos veinte del año dos mil once de catorce de noviembre

que sea una regulación especial no quiere decir que tenga que haber discriminación en la realización de ese empleo la señora garcía hablaba de que

llevan a cabo su trabajo en una situación penosa yo es que creo que hacer esa afirmación así

es que no tienen que realizarla en una situación penosa y si están realizándola en una situación penosa lo que

denunciarlo y arbitrar las fórmulas para que no se realice es decir hacer esa

primero que es una generalización que no se corresponde siempre con la realidad y segundo que en todo caso hay que articular los medios para que esto no sea así

nos hemos puesto de acuerdo precisamente en muchas iniciativas que se han traído a esta cámara exigiendo

condiciones en las que se esté realizando el trabajo por parte de las empleadas de hogar precisamente para que sean unas condiciones de máximo respeto hacia

etcétera la entrada en vigor como se ha dicho aquí también en dos mil doce de la ley que integra a las personas trabajadoras del hogar en el régimen general de la seguridad social para hacer emerger una parte importante del empleo de este sector en el año dos mil once y dos mil doce cuestión que también sucedió en euskadi aunque es verdad que

como dice ese estudio al que he hecho referencia a partir del año dos mil doce esas afiliaciones se han estancado no solamente en euskadi sino también en el resto de españa como décimos desde el uno de enero de dos mil doce ese régimen especial de seguridad social de empleados del hogar se integra dentro del régimen general y se integra como un sistema y la obligación de cotización cambia y a partir de ese momento se fijan tramos salariales a los que corresponden distintas bases de cotización y en función del salario que se percibe se debe de integrar en el tramo correspondiente y si se producen variaciones de salarios se deben comunicar a la tesorería general de la seguridad social con el fin de que se cambie

esta cuestión surge por una denuncia de las asociaciones de empleadas de hogar de que la

comunicadas y lo que se viene a reflejar en esa denuncia que

una dejación de funciones que se hace más evidente en el año dos mil diecinueve porque se incrementa el salario mínimo interprofesional y esto modifica

en julio del mismo año esas treinta y cuatro asociaciones pidieron una reunión con el responsable de la tesorería general de la seguridad social reunión que no se concedió

esa solicitud y no se le concede nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla la ley y la administración la tesorería general de la seguridad social debe de velar por el cumplimiento de esa ley

nosotros sí que estamos de acuerdo en ese sentido que si la tesorería general de la seguridad social considera que esas denuncias que se han hecho por parte de las asociaciones no son correctas porque se está aplicando correctamente la ley lo que debiera es contestar a las asociaciones diciendo que sí se está cumpliendo realmente la ley porque la ley debe de cumplirse y debe denunciarse cada caso concreto no solamente desde el punto de vista general sino también desde el punto de vista

se está dando un incumplimiento por eso sí que consideramos importante el que se dé una información a las trabajadoras

primer punto que se solicita lo que se viene a solicitar

eso nosotros consideramos que es una obviedad la primera parte de la solicitud y la segunda parte que es la cuestión de la retroactividad lo ha dicho la señora sánchez

porque no se puede exigir o los empleadores pueden alegar que

que no han prestado por lo tanto eso no es posible hacer la retroactividad de esa manera y por lo tanto yo creo que el objetivo que se pretende

la tesorería general de la seguridad social vele por el cumplimiento de esa ley con esa redacción de ese punto

con relación al punto dos que es eliminar esa discriminación

el sistema especial que hay en este momento cuenta con un tipo de cotización por contingencias comunes del veintiocho coma tres por ciento

profesionales y su equiparación al régimen general lo que vendría a implicar es la obligación de cotizar por desempleo por el fogasa y por la formación profesional eso ya está previsto que se haga

antes de esa integración completa del régimen especial de las empleadas de hogar al

los efectos que pueden tener para los empleadores y para las propias trabajadoras para que precisamente esa integración

para ninguno de ellos y con relación a los puntos de la enmienda a los puntos tercero y cuarto pues nosotros estamos de acuerdo por eso ya anuncio que nosotros lo que vamos a hacer es abstenernos en esa enmienda con relación

estamos de acuerdo con que el gobierno vasco haga esa campaña específica puede estar actuando yo no digo que no esté llevando a cabo actuaciones el gobierno vasco pero lo cierto es que todavía existen situaciones en las que

aunque tengo que reconocer que son las asociaciones las que y me consta además que son las que informan

están haciendo una labor importante pero yo creo que esa labor debe de hacerse por parte de las instituciones públicas con lo cual yo creo que reforzar esas campañas y hacer campañas específicas de información y campañas específicas de la inspección precisamente en este caso de la seguridad social para que se vea que se está bien cotizado pues consideramos que es correcto y con relación

con que algunas de las medidas ya se han adoptado de hecho

de las cuestiones que se pedía que era ese diagnóstico yo he tomado los datos

del propio gobierno vasco que se llevó a cabo o que se entregó al menos en mayo del dos mil diecinueve

nosotros vamos a abstenernos y con relación y ya con esto acabo de la enmienda del partido

de euskadi nos vamos a abstener también yo con lo de la convención de la oit lo dije en ese momento es importante de todas maneras el

no se puso a ello sino que hubo que esperar precisamente a los presupuestos y ahora está

yo creo que las propias asociaciones han venido o han puesto de manifiesto que gran parte de los derechos que están reconocidos en ese convenio ya están recogidos en la legislación española la cuestión es que ellos denuncian que en muchos casos

precisamente porque en ocasiones y hay que reconocerlo así las propias administraciones

antes que nada querría comentar el tema del convenio ciento ochenta y nueve que es una de las cosas que ya hemos pedido en este parlamento

entre todas entonces que sigamos posponiendo

se den mejoras en las situaciones de las trabajadoras del hogar a que en algún momento el gobierno de turno en el estado español

que sería seguir esperando mucho por supuesto que

pero como decía en estos momentos estamos trayendo una propuesta concreta una discriminación flagrante que se está dando contra este colectivo

como decía la señora llanos hay ya artículos y leyes

algunas de las partes que ese convenio trae redactado pero en este caso faltarían dos principales líneas de actuación que

de seguridad y de salud laboral y que por otra parte también se tomaran acciones para que las condiciones no sean menos favorables

en general en materia de seguridad social a eso hemos venido a hablar hoy y me parece que no se me ha respondido a lo que yo al menos he intentado explicar que puede ser

el problema es que estamos diciendo que estas trabajadoras no están cotizando por el salario mínimo que deberían que es un caso como comentaba la señora llanos que se ha dado a conocer sobre todo porque la subida del salario mínimo interprofesional en dos mil diecinueve ha sido eso ha hecho que las propias trabajadoras del hogar y los sindicatos se dieran cuenta de que estaba habiendo un problema a la hora de las cotizaciones

el salario mínimo interprofesional y entonces la base de cotización que tenían esas trabajadoras del hogar

estamos hablando de que no están cotizando en base a lo que debían que ha habido una parte

siete años en las que esas subidas no se han reflejado en las cotizaciones que ellas han tenido de eso estamos hablando no del salario estamos hablando de la cotización

nadie está hablando de que aquí el salario mínimo no haya subido es que de hecho nos hemos dado cuenta

ha tenido una subida en la que se ha demostrado que luego las cotizaciones no se estaban haciendo como se debieran hacer

porque no se ha cumplido la ley es que no estamos hablando de que aquí estemos pidiendo que se les suba el salario que se les pague no estamos hablando de que coticen como debieran haber cotizado todos estos años no lo han hecho os he dicho que ha habido diferentes

que haya una buena cotización y que haya una investigación en torno a esto y no esperar a que sean las propias trabajadoras del hogar quienes denuncien

el único empleo donde existe la palabra desistimiento y el despido sea tan barato es en el caso de las trabajadoras del hogar vamos a dejar de nuevo encima de ellas

cuando es el propio estado quien no está cumpliendo con su deber

eskerrik asko mahaiburu anderea pues la verdad es que lo ha explicado muy bien la señora etxebarrieta

porque para empezar nosotras cuando aportábamos en nuestra enmienda y luego en la enmienda de transacción que hemos firmado con ellas el cumplimiento del acuerdo de junio de dos mil dieciocho porque

las cosas que estamos acordando nosotros no hablábamos del diagnóstico sino del plan de trabajo basado diagnóstico que es la parte que nosotras en nuestra primera intervención apelábamos a que no estaba hecha a que no se realizaba y es la que pedíamos en nuestra enmienda

estamos de acuerdo en que es evidente que hay una situación de precariedad hay una situación de un colectivo

trabajadoras del hogar y es evidente que hay que denunciar pero al margen

es regular lo que hay que hacer es dar soluciones concretas y yo no he hablado de igual

relatando las condiciones de trabajo y el día a día de estas trabajadoras lo que estaba haciendo era denunciar y lo que estaba reclamando y creo que esta iniciativa además es parte concreta de estas soluciones por lo tanto si estamos de acuerdo en que hay una situación que es compleja que es complicada y que es de precariedad no tenemos que esperar a que sean las trabajadoras las que estén conquistando sus derechos y reivindicándose sino que nosotras entiendo que desde las instituciones tenemos que garantizar que sus derechos

estén dentro de unas condiciones de trabajo

con respecto a la enmienda de los partidos que sostienen al gobierno es que es verdad estamos de acuerdo y además ya lo hemos manifestado y ya viene de atrás con lo que proponen estamos de acuerdo con el convenio ciento ochenta y nueve del año dos mil once pero es que es insuficiente es que estamos todo el rato con ustedes perdidos en el

seguir avanzando y no podemos quedarnos ahí esa es una ratificación es un reconocimiento que ya se ha hecho es evidente

votarles a favor de su enmienda porque ustedes no quieren avanzar y hay una medida concreta

las que ya reconocimos en otro momento y me parece que además hoy en este pleno

porque son temas donde hay diagnósticos sobre todo parece que al menos en los discursos hay una voluntad de acuerdo

citando acuerdos que ya hemos hecho por lo tanto si los acuerdos ya están cerrados cumplámoslos y si no están

que hay una situación real por lo tanto vamos a aplicar nuevas medidas porque lo que ya hemos reconocido está ahí

por lo tanto creo que hay que centrarse en el tema concreto y

hay un problema con las cotizaciones además es un colectivo como ya hemos manifestado muchas veces muy vulnerable con una situación

nosotras además siempre hemos defendido que no puede ir muchas veces las propias trabajadoras van por delante

de verdad nos pongamos a trabajar por un acuerdo con medidas concretas que sí les ayude en su día a día que realmente más allá

bueno señora etxebarrieta señora garcía ustedes indicaban que no se haga recaer sobre las denuncias de las trabajadoras

o problemas que pudiera haber habido en cotizaciones de empleadas de hogar pero es que no habría otra forma de poderlo

de que tuvieran de que efectivamente se hubieran producido esas diferencias

porque si son los empleadores los empleadores solamente pueden cotizar en periodo voluntario de pago hablando de cantidades que saldrían de los periodos voluntarios de pago con lo cual el empleador no lo puede realizar

no puede hacer una petición de liquidación per sé solamente la puede hacer la inspección de trabajo

se tiene que realizar a través de un acta de liquidación que tendrá aplicado porque la norma no lo permite de otra forma el recargo

y esa sería la única forma de poder efectuar una cotización con efectos retroactivos

otra posibilidad así que en todo caso debería si existen unas diferencias de cotización en cada caso individual debería efectuarse esa denuncia ante la inspección de trabajo para que se efectuara la liquidación correspondiente

de cuatro años que es lo que permite también la norma y si hay diferencias de cantidades solamente permite

lo que en todo caso se puede aplicar para pedir esos efectos retroactivos entonces no se puede pedir de otra forma no se puede pedir como lo están haciendo ustedes tiene que hacerse a través de la forma que yo le estoy diciendo por eso le he dicho que no vemos lo que ustedes han planteado ahí porque no es posible y va en contra de lo que marca la normativa actualmente vigente y luego la normativa establecía dentro de estos años

gradual evidentemente por la influencia tan grande que podía tener si de un año para otro tu

en el ámbito de empleadas de hogar un incremento de cotizaciones muy grande de un año a otro porque podría tener una repercusión negativa en el empleo

se produce sin realizar un incremento gradual que es lo que se ha ido realizando

ha sido el año que más incremento ha habido tanto en las retribuciones porque se ha producido un aumento importante del salario mínimo interprofesional que es el que se está aplicando y eso automáticamente se ha traducido en un incremento en las cotizaciones porque se tiene que estar aplicando ese salario mínimo interprofesional de novecientos euros y el que no lo esté aplicando no está aplicando lo que marca la norma puede ser denunciable pero la norma lo que establece es

no estamos de acuerdo con el planteamiento que usted ha puesto en ese primer punto y luego en los puntos siguientes

se han venido realizando un montón de actuaciones

y se han cumplido con las obligaciones y con

enmiendas que se han aprobado dentro de este pleno como ya

aprobar nuestra enmienda a la totalidad y es lo que nosotros vamos a defender y que

le propongo al resto de los grupos voten a favor de la misma eskerrik asko

es un proceso político inédito en la unión europea pero que sin duda va a tener ya está teniendo consecuencias tanto a nivel comunitario como estatal como a nivel regional

afecta y va a afectar sin duda a euskadi tanto si hay acuerdo como sobre todo si no hay acuerdo entre el reino unido y la unión europea y estas consecuencias van a ser no solamente a nivel económico sino también a nivel social

ha desarrollado diversas iniciativas para analizar el impacto a nivel económico en nuestras empresas de un brexit con y sin acuerdo y la realidad es que ha puesto una serie de medidas a disposición de la empresas vascas tanto para su información como para su apoyo

sin embargo las medidas que se han puesto a disposición de las empresas vascas no han sido las mismas que se han puesto a disposición

tener en cuenta que las consecuencias del brexit no solamente se van a producir a nivel económico sino también a nivel social hay muchas personas viviendo en el reino unido o británicas viviendo en españa hay vidas hay proyectos vitales hay planes y hay expectativas que sin duda algunos o muchos de ellos se van

especialmente hoy nos interesa desde nuestro grupo hablar de esas expectativas de esos proyectos cebrados que pueden resultar en el ámbito de la investigación

en el ámbito de la investigación de la ciencia y de la tecnología y la innovación vascas existen a día de hoy muchos

con fondos europeos entre universidades pymes e instituciones vascas con el reino unido yo tengo aquí unas cifras que pedí en su día

proyectos por valor de treinta y seis millónes de euros desarrollados a día de hoy por las universidades vascas veintitrés coma seis millónes de euros en proyectos de investigación de vascas en el reino unido y hasta once millónes de euros invertidos en proyectos de investigación de instituciones vascas muy diversas el brexit conlleva que esta financiación europea desaparezca y las alternativas son una que sea el reino unido quien asuma esa parte de la financiación o dos que si el reino unido no asumen esa financiación estos proyectos vean cuestionadas su viabilidad por falta precisamente de financiación

una de las primeras propuestas que lanzamos y que tengo que adelantar hemos conseguido acordar con los partidos que representan al gobierno sea la de reforzar los mecanismos de los que dispone el sistema vasco de ciencia y tecnología en cuanto a financiación para dar a esos proyectos científicos la estabilidad

pero como he dicho al principio de mi intervención no solamente necesita certidumbre y estabilidad los proyectos científicos y las empresas sino que también lo necesitan las personas y de ahí que la segunda

a la que nos queremos referir en nuestra iniciativa sea la del futuro de las personas investigadoras que ahora mismo están desarrollando su labor en el reino unido

que ha estado siguiendo de cerca las negociaciones del brexit y analizando su impacto entre la comunidad científica española las encuestas que han realizado

es un entorno menos atractivo para investigar que antes del referéndum sobre el brexit consideran estas personas encuestadas que como digo están trabajando en el reino unido que de moverse a otro país casi la mitad se mudaría a españa

y que aunque alrededor del cuarenta y cinco por ciento va a esperar al resultado de las negociaciones para decidir sobre su futuro profesional cerca del veinticinco por ciento ya ha cambiado sus planes sobre su permanencia en el reino unido

un veinte por ciento se marchará del país en menos de doce meses quiere decir esto que si bien el brexit es una amenaza para estas personas investigadoras

y también para este país para euskadi si somos capaces de ver esa oportunidad delante de nuestras narices

tenemos que atraer ese talento tenemos que atraer ese talento investigador proporcionándoles la información necesaria para que sepan qué herramientas tienen para volver a euskadi

las ayudas que ofrecen los programas actuales en especial

tenemos una tercera cuestión que nos interesa y nos importa y es en qué situación quedan todos aquellos estudiantes que

y diferentes programas de enriquecimiento personal pero también de enriquecimiento formativo y educativo en el reino unido consideramos que no pueden quedar al margen

y las universidades del reino unido para que todos esos estudiantes que a día de hoy que desarrollan esos programas erasmus

esta actividad con una cierta normalidad dentro de lo que el brexit nos va a implicar por lo tanto a mí me gustaría terminar esta breve intervención diciendo que bueno que para hacer frente al brexit igual que para hacer frente a otros vaivenes que sucedan en el ámbito comunitario en el ámbito mundial

y ampliemos también el paraguas hacia quienes un día pudieron abandonar nuestro territorio en busca de una mejor perspectiva laboral o incluso profesional o formativa y

creo que proteger la economía no es solo proteger a las empresas es también proteger a las personas que están impulsando esa economía y las personas que desarrollan proyectos de investigación las personas que desarrollan tareas investigadoras

hoy concretamente en el reino unido creo que son personas importantes también para la economía vasca baina ez da ekonomia

gracias presidenta buenos días lehendakari consejera señorías menos mal que

se ha dado cuenta de que hay brexit y de que hay que tomar medidas

trata de preocuparse por los investigadores vascos vascas en el reino unido pero no lo hace de una manera integral desde nuestro punto de vista completado buena parte de su iniciativa con algunas otras cuestiones porque el trabajo se ha hecho y trabajo se viene realizando desde que los ingleses decidieron abandonar la unión europea en relación con estas cuestiones y eso también

y es bueno hacerlo y es bueno buscar coordinaciones y colaboraciones y esa es nuestra intención en

de una manera integral el abordaje de esta cuestión y no lo ha conseguido tampoco en la transacción supongo que habrá tenido alguna dificultad pero es decir aprovechando todas las oportunidades los investigadores de información de asesoramiento de actuación de posibilidades futuras que están en su mano

lo que ya les ofrecen las instituciones y lo que pueden coordinar entre muchas instituciones eso es lo que hay que también sobre lo que trabajar en esa coordinación en esa colaboración usted habla del gobierno usted habla de la universidad del país vasco yo hablo de los gobiernos

del gobierno de españa del ministerio hablo de las universidades de las nuestras pero también hablo de las del resto de europa no solamente de las británicas porque es una labor

se ligan a proyectos de investigación también de las empresas lógicamente pero no solamente de las vascas

esta red europea donde los investigadores podrán jugar y podrán hacer su vida y sus cuestiones científicas y sus

es que a veces viendo estas iniciativas que solo se concretan a lo nuestro a las oportunidades que nosotros tenemos que les damos que vienen es decir viendo su iniciativa debemos de considerar que aunque

de un entramado que es mucho más potente que el empezar a ver solamente

estamos haciendo sino que y además sí que lo tenemos que hacer pero hay que ser más ambicioso y hay que hacer un planteamiento un poco más general y un poco más

innovación y universidades que ya ha hecho cosas también por qué no integrarnos en esos esfuerzos que reclamamos y que podemos hacer con otras instituciones que ya llevan trabajando

pero hay que reconocer y dar utilidad a las que ya existen también aparte de la que usted quiere implementar

son servicios de asesoría son servicios de comunicación existen y se lleva trabajando

la actividad de los trabajadores en el reino unido no solamente de los investigadores sino de todos desde que se aprobó

en el reino unido en ese sentido en marzo del dos mil diecisiete por parte

del partido popular o sea que ha tenido continuidad con los siguientes gobiernos con el siguiente gobierno o sea que en ese sentido

enmienda de totalidad queremos reconocer que la participación y la colaboración es interesante en ese momento y además

lo normal es que los investigadores dentro de los diferentes proyectos de investigación en los que participan

de la unión europea proyectos de investigación de empresas proyectos de investigación de otros ámbitos

de proyectos de investigación que ya no son europeos exclusivamente es decir e investigadores que desarrollan con contratos de trabajo su investigación sigan allá sigan allá

que habrá que ver las posibilidades en otros casos con los problemas de residencia con los problemas de contratos de trabajo es decir

lo normal es que esos investigadores sigan allá hasta que acaben sus trabajos

de programas acaben sus trabajos y se queden allá con normalidad porque les interesa a las empresas de allá que vayan a otros sitios donde encuentren además proyectos de investigación

y a su medida no todos estarán en euskadi señor becerra habrá muchos proyectos de investigación

en coordinación con otros gobiernos con los gobiernos de otros países de la unión europea con el gobierno de españa con otras universidades que también de decir en esa red que hay que tejer mire los

usted establece una posibilidad de hacerlo de una mayor manera

lo han podido hacer desde que se abrió la embajada de españa en londres

además para qué para muchas cosas para muchas cosas porque no solamente es para

para consultas particulares por supuesto pero es para lo que se ha hecho para

informativas sobre posibilidades de trabajo de actuación asistencia además personalizada en relación con muchas de estas cuestiones o sea no solamente marcos generales si no ese es el elemento fundamental

y de atenciones personalizadas en relación con lo que se puede hacer y además desde un primer momento

de esas cuestiones son de las que se habla en esos grupos y en esa capacidad de actuación

los grupos de investigación española que participan en programas de horizonte dos mil veinte pues se dan respuestas y se organizan grupos de trabajo y además

de científicos españoles en el reino unido donde están la inmensa mayoría y donde hay

es uno de los agentes con los que cuenta esa oficina que interactúa con los científicos y con los investigadores de una manera continuada es decir

espacial ahí están se está trabajando sobre eso qué impacto tendrá el brexit sobre la participación del reino unido en el próximo programa marco horizonte europa

para que se queden los investigadores españoles en este caso los investigadores vascos

en el reino unido en la medida que sea posible y en la medida que

de analizar cuando eso no pase en cuanto a la universidad del país vasco y a sus menciones claro que es importante y a las otras universidades deusto

trabajando y también pensando en qué oportunidades puedan tener de retornos de científicos o de

que también lo hará en su capacidad de autonomía

pero en sentido nosotros también qué es lo que reclamamos no solamente eso y

con otras universidades no solamente del reino unido porque aquí hay una sinergia en relación con la investigación de reino unido de otras universidades de la unión europea por supuesto las universidades

íntima relación con los estudiantes vascos y ese es el elemento fundamental que nosotros queremos poner en valor hay que coordinar hay que coordinar

de nuestras instituciones de nuestro gobierno y de su capacidad de actuación además se me ha olvidado no me cabe ninguna duda de que ikerbasque ya está trabajando también en eso que se le pide en esta iniciativa se está trabajando seguro porque es

fichar a los mejores investigadores o a las mejores personas que tengan cabida aquí que tengan oportunidades aquí

totalidad que yo pensaba que podía llegar a una transacción pero como no ha pillado nada de lo que yo le he propuesto pues la verdad que no me agrada mucho y entonces me voy a abstener

que ya le he explicado que se pueden reconocer se puede reconocer que hay que participar también de una manera en las estrategias del ministerio de innovación de

y además no sé por qué el partido socialista no ha empujado un poco más a que se recoja esa colaboración y esa participación

acabo inmediatamente única donde la asociación de científicos españoles
es uno de los agentes más importantes en relación con la investigación o sea eso amaitu mesedez
el otro aspecto era lo de la universidad del país vasco y el resto de universidades que tienen que participar con las de reino unido sí

gracias presidenta bien como ya se ha dicho por el señor becerra

de euskal herria bildu el personal investigador que es de lo que estamos hablando en su conjunto

para nuestra sociedad la innovación la ciencia y la tecnología y es clave en una sociedad que avanza a veces a ritmos vertiginosos es clave para el conocimiento para el avance para una sociedad que convive en un mundo plural globalizado y es clave como herramienta de progreso social porque el conocimiento en este sentido es la mayor virtud el conocimiento es el elemento cohesionador el que contribuye al bienestar económico y social del país

porque sin investigación no hay avances no hay evolución ni hay creación del conocimiento por ello es imprescindible que la relación del sistema universitario vasco con los centros de investigación y las universidades del reino unido se mantengan como lo venían haciendo hasta la fecha se sigan materializando proyectos de investigación

de colaboración además de reforzar mediante becas o ayudas tanto para el alumnado como para el profesorado para que puedan seguir desarrollando actividades en reino unido de eso habla básicamente la enmienda que hemos pactado que en parte ya

el conocimiento es lo que nos hace ser libres y por tanto los recursos son importantísimos y esenciales este es el principal problema que existe qué pasaría si ciertos proyectos dejan estar financiados por la unión europea

con la universidad pública vasca o con el resto de la red universitaria vasca se debe estudiar por tanto la posibilidad de incrementar los fondos

las universidades o las entidades públicas determinar exactamente la situación del personal investigador en el reino unido

es muy complicado es complicado fijar el impacto cada una de las variables que puedan afectar a los investigadores e investigadoras porque aún no se sabe siquiera

pactado acordado o no eso está todavía

si se aprueba el acuerdo alcanzado los ciudadanos europeos

las mismas condiciones antes de finalizar el periodo de transición que es el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte el gobierno español ha aprobado el real decreto ley

ante la retirada del reino unido sin que se haya alcanzado un acuerdo entendiendo que la migración y la extranjería son competencia de la administración general

aun así el gobierno vasco se ha ocupado y preocupado de analizar el impacto que pueda tener el brexit en distintas áreas no solo en las empresas vascas que exportan al reino unido como sabemos el reino unido es uno de los principales socios comerciales de las empresas vascas como por ejemplo la repercusión en la población vasca que reside o se desplaza al reino unido

además el gobierno vasco mantiene relación directa con el gobierno de españa interlocución con la embajada británica en españa que como decía el señor barrio lleva casi dos años con una

una comisión creada para afrontar el nuevo escenario y adaptarse al mismo analizando las importantes repercusiones del brexit en el ámbito institucional social y económico

el gobierno vasco tiene una labor que a nosotros nos parece fundamental que es informar a la sociedad vasca afectada sobre sus derechos y facilitar cauces con las instancias competentes también la agencia vasca de internacionalización a través de la web y con apoyo de una oficina en londres ha puesto en marcha un servicio de información

a las empresas vascas para que las empresas puedan analizar su grado de exposición ante este fenómeno como también sería recomendable que esa oficina se utilizase también como vía o canal para informar sobre las oportunidades de empleo existentes en el sistema vasco de ciencia tecnología

con el fin como decía el señor becerra de atraer talento también a nuestra sociedad existe también en el departamento de educación un programa en relación con el retorno de personas investigadoras vascas que están trabajando en empresas o instituciones del reino unido un programa de repatriación del personal de investigación horregatik ikerbasque research fellows creo que lo hemos mencionado todos que está dotado de recursos y del que debiera ser un análisis

y lo más importante es el acuerdo que hemos llegado hoy en torno a la ciencia la tecnología y la innovación

y el debate al fin y al cabo se fija en apostar por una sociedad del conocimiento de la investigación que avance y que sea competitiva con el resto de españa europa e internacionalmente también yo

en esta materia y me alegro que el señor barrio al menos no vote en contra de esta propuesta aunque la considere en cierto modo

de los últimos años meses hemos visto como el proceso iniciado por el reino unido en dos mil dieciséis ha ido

cada vez más hoy más de tres años después desde entonces la situación sigue repleta de incertidumbres no solo para los propios británicos sino también para países que puedan tener como euskadi intereses de todo tipo en reino unido afectando a instituciones afectando a personas a empresas y además de todos los

relacionados entre sí creo que también lo están con el objeto de la proposición no de ley presentada en este caso por elkarrekin podemos son la investigación de excelencia y la internacionalización

hasta el refuerzo de los grupos de investigación de excelencia y la competitividad del sistema vasco de ciencia y tecnología e investigación en el marco del espacio europeo de innovación

en estos ejes también dentro del plan se identifican acciones objetivos concretos sobre todo la potenciación de la movilidad del personal investigador y la participación en el espacio europeo de investigación también en lo que respecta a aquellos

en reino unido y no solo el gobierno vasco es quien puede estar poniendo el foco en estos dos aspectos sino también las propias universidades de nuestro sistema reconocen el reto que tienen por delante para promover la internacionalización de la investigación en el marco del espacio europeo de investigación

los retos las acciones que tienen previstas y entre ellas pues destaca sobre todo la captación de propuestas competitivas o potenciar el posicionamiento

en los diferentes consorcios y redes de investigación de excelencia

en reino unido siendo esto así vista la importancia que tiene la investigación de excelencia para euskadi en el ámbito internacional la incertidumbre en torno al desenlace del brexit un brexit sobre todo sin acuerdo

con certeza de qué forma va a afectar a la ciudadanía vasca sobre todo en reino unido sin embargo y se ha comentado también el gobierno vasco así como otras instituciones

contingencia planes específicos y lo han hecho además en diferentes ámbitos para tratar de dotar a la ciudadanía vasca de un

a la incerteza que genera el brexit lo han hecho en materias como derechos de residencia asistencia sanitaria educación

homologación de títulos etcétera y creo que gracias al acuerdo transaccional hoy

de la educación pues damos un paso más y en el acuerdo firmado con elkarrekin podemos con euskal herria bildu y con el grupo socialista pues bueno ampliamos ese paquete medidas ese paquete planes y lo hacemos aplicable también a los investigadores e investigadoras vascas en este caso en reino unido

en cinco puntos los aspectos que creemos fundamentales para como digo ante un contexto de inseguridad ante un contexto de incerteza dotar de seguridad dotar de garantías

a leer los cinco puntos pero bueno sí que creo que es un buen acuerdo para euskadi es un buen acuerdo para los intereses

y creo que hoy es lo más importante creo que es un buen acuerdo para las personas investigadoras vascas en reino unido y por lo tanto supone una base o un respaldo de nuestras instituciones y también de esta cámara y por lo tanto de la sociedad vasca a este colectivo de investigadores

a esta transacción que sin duda creo que hoy merece la pena poner en valor

ha sido nuestra intención

de un posible acuerdo pero tenga en cuenta dos cuestiones importantes la primera es que en nuestra propuesta original nuestra proposición no de ley interpelaba al gobierno vasco mi labor aquí como parlamentario es controlar la acción del gobierno y en aquellas cuestiones donde yo detecte

estime oportunas y así lo hemos hecho no he querido diluir esta cuestión porque

entendía y entiendo que es el gobierno vasco quien tenía los instrumentos más eficaces y más oportunos para hacer frente a esta cuestión

ha centrado su enmienda en el papel del ministerio de ciencia innovación e investigación y claro

y hagan uno con la estrategia del ministerio eso está muy bien y efectivamente tendrán que hacerlo pero no puede ser eso la cuestión central de este tema también deberíamos plantearnos llegado a este punto cuál es el papel que tiene el ministerio porque no crea que

antes no hemos tenido en cuenta las iniciativas que pudiera estar desarrollando el ministerio usted

tengo aquí una respuesta dada por el propio ministerio a algún representante parlamentario de nuestro espacio político en enero de dos mil diecinueve

cabe señalar que la fundación española para la ciencia y tecnología publica anualmente la colección

science in spain con oportunidades europeas nacionales

una publicación anual a usted le parece suficiente como para considerarse la información que necesita el personal investigador de cara a su posible retorno más adelante dice el propio ministerio las actuaciones de atracción de talentos son las existentes con carácter general

existen en la actualidad medidas diseñadas específicamente para el reino unido esto es enero de dos mil diecinueve no crea usted que yo no he tenido en cuenta cuál es el papel mejorable sin duda del ministerio en esta cuestión pero no he querido hacerlo centro de la iniciativa

o que quizás he entendido mal en su intervención por un lado viene a decir que se está trabajando para que los investigadores se queden en el reino unido si es que yo lo que quiero es que vuelvan yo lo que quiero es que vuelvan

en cuestión la necesidad de esta iniciativa claro cuando en una transacción nos encontramos a los grupos que sostienen al gobierno firmando poner en marcha un servicio de asesoría dentro de la oficina en londres de la basque trade investment

incrementar los fondos procedentes del sistema vasco de ciencia y tecnología impulsar convenios bilaterales pues uno se encuentra que no es lo de seguir trabajando lo de seguir impulsando sino que es que hay cosas nuevas que procedía hacer es decir esta iniciativa era es

a los grupos que soportan al gobierno al señor álvarez al señor pastor

no se limiten a aprobarla sino también a hacerla real que es lo que necesitamos gracias eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularra barrio jauna

sí gracias presidenta con su permiso desde el escaño

de lo del señor becerra iba un poco más allá es decir

y yo he dicho con esta iniciativa que le quería dar trabajo al gobierno o deberes y yo además lo quería hacer en coordinación y le quería poner como elemento fundamental de esa interpelación y de esos mejores deberes el hacerlo en el ámbito que hay que hacerlo porque las relaciones y las cuestiones de la unión europea y el brexit es un problema para la unión europea forman parte también de la actividad de los estados con normalidad y entonces en ese sentido esta parte que somos el país vasco lo que mejor

además de sus propias potencialidades y capacidades y competencias hacerla en colaboración y en cooperación por eso esa colaboración esa cooperación yo se la reclamo al gobierno vasco y se la reclamo a

en lo que yo quería decir en ese papel esencial de los estados en relación con el brexit en cualquier caso me ha dicho que no que yo quería poner

lo que yo decía pero es que no ha sido ni una cuestión marginal señor becerra es que usted no me la ha puesto ni marginalmente no solamente de una manera central yo es que esperaba que lo iba

encontrado un acomodo un cauce a la coordinación a la mejora de relaciones al aprovechar los esfuerzos que se están haciendo que usted ha dicho que bueno que

los ha criticado de alguna manera pero nosotros y yo he hecho referencia

de científicos españoles en el reino unido en relación con el papel que está llevando para preservar para garantizar para hacer para dar respuesta a muchas de esas preguntas que yo he hecho y que tienen respuesta precisamente por el trabajo de estas

es que los investigadores vascos estén donde tengan que estar si tienen que estar en el reino unido y hacer allá sus mejores trabajos de investigación y ser los mejores científicos

mejor pero la labor fundamental es que encontrar las mejores posibilidades aquí o en el resto del mundo
para que los investigadores los científicos vascos hagan su mejor papel muchas gracias eskerrik asko rodríguez jauna álvarez jauna